aurrekonturik altuenak ez dakit zenbat bider izan dugun ekitaldiekin ere y es que el hecho de ser los más altos solo significa que se tiene mayor previsión de gasto solo eso cuánto pero habrá que ver y analizar el cómo y el para qué se destina el montante presupuestario algo que desconocemos

datos e intenciones las hemos conocido a través de los medios de comunicación algo a lo que

porque seguramente si esto hubiese ocurrido también hubiesemos hecho frente a la pandemia que estamos padeciendo

desde otra realidad y en parámetros de mayor fortaleza de los

septiembre el fmi pide subir impuestos a los ricos para financiar el aumento de gasto público en octubre confebask

pueda hacerlo y es que y es que solo

en europa solo cuatro países europeos recaudan por ejemplo menos que la comunidad autónoma vasca con el impuesto sobre las

el gobierno británico planea una subida de impuestos a las rentas altas empresas y ganancias de capitales para hacer frente a la crisis del coronavirus

millónes de euros dinamarca presenta proyecto de impuesto a las grandes fortunas y los bancos

la tasa de las transacciones financieras o la tasa

en primer lugar decir que aunque en la proposición en el segundo punto y seguramente que lo que me sea más noticiable

la tasa covid y la propuesta de poner en marcha este recargo extraordinario fruto de la situación

económica y social derivada de la misma en realidad cuando estamos hablando de la modificación de la política fiscal en euskadi estamos hablando de un elemento estructural que

en esta legislatura como en la anterior consideramos que el sistema tributario la política fiscal que mantiene el gobierno vasco así como las diputaciones es equivocada porque en los últimos años

se ha basado básicamente en generar las condiciones perfectas para atraer inversión privada rebajando los tipos

no haciendo a su vez por cierto que esto sí sería en términos liberales

no haciendo a su vez rebajas fiscales a quienes menos tienen

menos tienen y a su vez se ha ido rebajando la presión fiscal tienen es decir básicamente se han incumplido los preceptos más básicos de una política fiscal progresiva eso es lo que

en los últimos años con un deterioro muy importante de los servicios públicos de la capacidad de ingreso del gobierno vasco a su vez eso condicionado por la imposibilidad de endeudarse por las políticas austericidas de los últimos años

a la situación de complicación económica vivida y también ha deteriorado lo oportunidad y la capacidad y las herramientas ahora

y las dificultades derivadas de la misma para implementar

fruto de la capacidad y de las herramientas de recaudar más y mejor la propuesta que se plantea en la transaccional

de plantear una reforma estructural en términos fiscales ayer el consejero azpiazu decía que

a una reforma fiscal en euskadi eso sí darle vueltas como si fuese una noria pero poniendo

por delante y es que en ningún caso mediante subidas

nos genera ciertamente un desconcierto porque no sabemos en qué dirección

fiscal que poco aclara el señor consejero y que desde luego por las intervenciones que ha tenido en el parlamento vasco así como en las comisiones en las que ha tenido a bien comparecer no va a ir en la dirección planteamos no parece que pretenda hacer caso o por lo menos plantearse la posibilidad de aplicar ciertas propuestas que planteamos en la reforma fiscal que presentamos hace ya un mes

ninguna observación en ese sentido por parte del consejero

que la reforma fiscal que se pueda plantear y que también venía comprometida en el acuerdo de gobierno

en la dirección de subir los impuestos a quienes más tienen a las grandes corporaciones

y a las grandes fortunas y desde una lógica además que consideramos equivocada

en un momento de recesión económica el ahorro privado que se retraería y que iría a la inversión productiva del país pues se vería condicionado y por tanto impediría esa recuperación económica y consideramos que es falso

la propuesta de reforma fiscal que plantea elkarrekin podemos cuando aborda

el ahorro privado del que se habla en realidad no es un ahorro privado que derive en inversión productiva en el país sino que es ahorro privado que por lo general suele ir a los mercados financieros y a cotizar en bolsa en ningún caso a la economía real y material en euskadi y por tanto

en la que se basa el gobierno vasco para no contemplar o en este caso el señor consejero para no contemplar subidas impositivas es

bajadas impositivas o aminorar la carga a quienes menos tienen

al señor consejero sí que se ha hablado de que estamos ante los presupuestos con mayor previsión de gasto de los últimos años

con qué lo compara o con qué años o con qué ejercicios lo compara el gobierno vasco claro si nos referimos

ejecutado existe un incremento pero es que cómo no iba a haber un incremento en nuestra opinión es un incremento de cinco coma siete por ciento a nivel

de economía de guerra como estamos viviendo y teniendo en cuenta que las reglas

aún más valiente en la capacidad de gasto público para que lo público lidere la recuperación económica

de gasto en el presupuesto del dos mil veintiuno pero consideramos que debiese de haber sido o debería de haber sido mayor esto claro poniendo encima de la mesa también la necesidad de que tenemos que examinar el presupuesto

esa política de gasto dónde van estos incrementos de gasto público que el gobierno vasco plantea porque a día de hoy pues como se decía antes salvo ciertas

de analizar exactamente los presupuestos ya tendremos ocasión en su momento

respecto a ellos y también respecto a la política de gastos y de ingresos también se ha mencionado en la intervención anterior que no somos nosotros los únicos que planteamos

recargos extraordinarios en el nivel de los territorios históricos

planteando la necesidad que ante la precariedad galopante

de evitar la austeridad y de impulsar desde lo público la recuperación económica hay organismos internacionales de corte

no entendemos por qué euskadi debería de ser diferente en este sentido

el gobierno vasco asuma como ha asumido por lo menos en términos de retórica el fin de la austeridad

encorsetamiento del gasto público que también eso que ha asumido en términos retóricos también lo asuma en términos materiales irreales y también asuma la necesidad de subir impuestos a quienes más tienen para dar cumplimiento a lo que es un principio básico de la política fiscal de que es la progresividad para poder paliar la complicada situación que en estos momentos vive mucha parte de la ciudadanía vasca y

gracias presidenta egun on guztioi los socialistas vascos no estamos de acuerdo con la proposición no de ley presentada por el grupo eh bildu
por los siguientes motivos en primer lugar porque entendemos que no es el momento de una reforma fiscal

una reforma fiscal en euskadi de forma urgente como se plantea orientada a subir impuestos

lo que puede conllevar un retraso en la salida de la crisis la revisión de la fiscalidad requiere primero una evaluación y reflexión compartida con las instituciones competentes porque pretendemos que esa revisión fiscal sea adecuada a la nueva realidad

y el apoyo a la economía generadora de empleo ahora mismo el gobierno vasco está en el planteamiento del incremento del gasto público

y la financiación de las políticas públicas en el ámbito de los ingresos para los presupuestos de dos mil veintiuno

unos mayores ingresos presupuestarios vía aportaciones de las diputaciones forales y la suspensión de las reglas fiscales por parte de europa lo que permitirá equilibrar

y la reducción de las aportaciones por tanto esa revisión de la fiscalidad vasca podrá materializarse cuando las circunstancias económicas mejoren y permitan ese debate sosegado que esperamos que sea lo antes posible en segundo lugar porque se han puesto en marcha de diferente tipo y desde diferentes estamentos institucionales a los sectores y empresas más afectadas desde marzo se ha puesto en marcha la red de seguridad con un impacto muy significativo tanto a nivel de gobierno central

se han movilizado líneas de créditos y avales sobre todo a pymes y autónomos

y las prestaciones por cese de actividad a los autónomos que son ayudas directas a las rentas a las empresas y a las familias la hostelería restauración y comercio minorista son los que tienen una participación más importante en los avales del ico

el compromiso del gobierno central y del gobierno vasco para apoyar el tejido productivo y el empleo es claro además se sigue estudiando y aprobando acciones adicionales para reforzar esa red de seguridad en las semanas duras que nos quedan por delante en tercer lugar

la concertación de nuevos impuestos la evolución de las modificaciones impositivas en el modelo tributario español

y su peso en los ingresos en los próximos ejercicios hace que debamos ser prudentes antes de tomar iniciativas propias

por la dudosa aplicación de una tasa desde un punto de vista de repercusión económica y horizonte temporal estas propuestas de recargos tasas o incrementos de tarifas

no permite cuantificar ni estimar de manera mínimamente rigurosa el impacto económico de las medidas fiscales propuestas pues el escenario económico que resulta de la extrapolación de los datos de los que se dispone referidos a ejercicios anteriores distan mucho del contexto económico actual

la aplicación de dicha medida y sus resultados no serían de aplicación inmediata a diferencia de las ayudas directas que sí se están poniendo ya en marcha quinto

en las juntas generales por lo menos en dos de los tres territorios y se ha rechazado este planteamiento para terminar volver a insistir en nuestro compromiso de

primando la evaluación de los resultados y el impacto de las medidas implantadas con respecto a la reforma que acordamos en dos mil trece y dos mil dieciocho estoy convencida de que cuando llegue ese momento podremos participar y realizar importantes aportaciones por parte de todos los grupos representados en esta cámara y confío

ya que pienso que compartimos los principios de progresividad y de justicia social en los que debe basarse un sistema fiscal justo equitativo y suficiente

egun on sailburuok jaun andreok egun on guztioi después del intenso día de ayer hoy venía con el espíritu navideño

creo decididamente que es el momento de aunar fuerzas ya lo dije ayer y dejar a un lado la escenificación y la confrontación nuestra función será aunar cauces para que la gente de euskadi avance para que superemos la adversidad de una pandemia y que con el compromiso individual y colectivo garanticemos la salud de todos recuperemos

y para que volvamos a avanzar como país tengo claro que en esta cámara no todos tenemos el mismo objetivo

sobre la reforma fiscal no voy a profundizar como ya he dicho antes pues ya lo hice el doce de noviembre en este pleno en relación con la necesidad de abordar una reforma fiscal

de la iniciativa de eh bildu y así también lo recoge la transaccional con podemos ya conocen nuestra postura reforma fiscal sí pero no ahora primero

reforma fiscal en dos mil dieciocho segundo cuando esta situación se suavice habrá que ver todas las consecuencias que nos ha dejado y tercero

ese es nuestro compromiso recogido en nuestro programa de gobierno

pero sí le reitero el compromiso de revisar la fiscalidad y también reforzar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal

no debemos obviar que esta revisión fiscal también se debe plantear en un panorama de política fiscal verde alineada con la unión europea el incremento de recaudación fiscal

debería tener como destino principal la realización de inversiones públicas

y los residuos así como luchar contra el cambio climático

consideramos que una subida de impuestos en estos momentos generaría empobrecimiento y podría poner en peligro la demanda

esta tasa no es efectiva es limitada debemos esperar a tener una visión de conjunto para entonces actuar y proponer va

tenemos que adoptar medidas de relanzamiento y cobertura social por tanto reforma fiscal sí pero una vez veamos los resultados de la reactivación económica y social a través de nuestros programas

o los presupuestos valientes del dos mil veintiuno que el gobierno vasco presentará acaba de presentar hoy en el parlamento vasco y en esta línea nuestra enmienda

y que me parecen interesantes que debiéramos comentar

por qué el grupo podemos siendo parte del gobierno español propone para el territorio común una subida puntual de impuestos y en euskadi una profunda reforma fiscal

que frente a madrid sí grava el patrimonio y que también grava las sucesiones y donaciones

que el estado no lo recoge ni lo plantea en su modificación tributaria puntual por tanto por qué esas diferencias

profundo y sosegado algo en lo que vuelvo a recordar también ha coincidido el banco de españa indicando que hubiera sido preferible retrasar la introducción de las modificaciones tributarias estatales

sobre la política fiscal a aplicar en respuesta a la crisis de la covid en cada una

en este informe de la ocde que trata específicamente como decía

establece como decía diferentes políticas fiscales a aplicar en diferentes fases de esta crisis entre las medidas y ayudas a ofrecer en el período de confinamiento y en la de restricción de la actividad económica lo que recoge que las políticas fiscales deben estar coordinadas con la política monetaria en combinación con el acceso a prestamos a tipo cero y a otras ayudas que fomenten la liquidez hori ere egiten dugu y propone en la parte fiscal y aquí lo que hoy tratamos la posibilidad de soportar los aplazamientos con la reducción de tipos e incluso la exención de algunos impuestos o sea que la subida de impuestos iría en contra a las propuestas o a las directrices que establece la ocde y solo en la fase de recuperación que sería la siguiente fase a la estaríamos ahora

el hecho de que la eliminación de las medidas no suponga un incremento desmesurado de la carga fiscal

urgente en euskadi y en españa no muy ilustrativo a este respecto es que en la presentación de los presupuestos generales del estado para dos mil veintiuno el gobierno del que ustedes son parte dijeron que no abordaría una reforma tributaria en profundidad hasta no superar la actual crisis sanitaria y recuperar la estabilidad económica

necesaria una reforma fiscal urgente y en territorio común no

reflexiones que también traslado a eh bildu puesto que en el debate anterior no tuve respuesta y

y como último punto sobre la necesidad de una reforma fiscal para poder elaborar unos presupuestos expansivos pues

el gobierno yo lo he explicado aquí y el sailburu en muchas ocasiones

sin tal reforma fiscal son unos presupuestos valientes expansivos y sin recortes en salud educación y políticas sociales

por lo que espero que podamos hablar analizar las propuestas de todos los partidos políticos y en particular al grupo elkarrekin podemos que tras revisar la documentación enviada el pasado jueves

habéis podido observar que el gobierno vasco ha cumplido razonablemente con el compromiso para los presupuestos dos mil veinte somos conscientes de las dificultades que vivimos que exigen priorizar los acuerdos pero es el momento de aunar fuerzas de pasar de la escenificación a la materialización de acuerdos beraz badakizuenez zuekin egon jarrerak hurbildu

gracias señora presidenta buenos días a todos y a todas presentan hoy de nuevo el mismo debate que siempre que tienen ocasión vienen a denunciar subamos los impuestos subámoslos porque si subimos los impuestos se va a recaudar más al final todo es muy sencillo ustedes suben los impuestos

y finalmente las arcas del estado se llenan para pagar los servicios que nos prestan qué puede salir mal hagamos una breve lista no es cierto que subiendo los impuestos se recaude más ustedes saben que el equilibrio recaudatorio es complejo

locas pues lo que puede pasar subiendo los impuestos es que lejos de lo que pretenden consigan finalmente recaudar menos quiénes son los que más tienen lo más probable es que esos que más tienen terminen siendo las clases medias españolas y las pymes volverán a cargar las tintas en los de siempre esos que ya a bastantes cargas fiscales se ven sometidos entiende la sociedad otro impuesto

el mastodóntico gasto político está muy presente en los vascos saben y de sobra el despilfarro que tienen nuestra administración y además quieren imponer un impuesto más sin proponer ni un solo recorte en la clase política vasca hay muchas más dudas pero el tiempo es finito

una alternativa que pasa por el ejemplo palpable y reconocible de lo comentado de la mastodóntica clase política vasca les invito a buscar

del mundo ya que hablan tanto de igualarnos a europa tienen un índice similar de políticos por habitante un índice similar de gasto político per cápita no lo hay pero no es casualidad la construcción de una nación

sueldo que además para que esta gente predique con el dogma la frase de napoleón

una nación imaginada requiere de doscientos veintiocho políticos

europeos de reconstrucción todo el mundo está trabajando en reactivar la economía incluido la parte del gobierno que le corresponde pero ahora su idea es subir

como decía al principio qué puede salir mal muchas gracias eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria

se nos plantea hoy una iniciativa estas iniciativas un poco estandarizadas que han presentado el grupo proponente en otras instituciones entre ellas la diputación foral de bizkaia cuyas cuentas generales pues ya la han desestimado

inmediata en la comunidad autónoma del país vasco de la tasa extra de covid entre los argumentos que se desarrollan pues hace referencia al gasto que ha supuesto

y demás y como soluciones se plantea el establecer un recargo a una serie de impuestos esta era la propuesta original y luego la transacción entre los dos grupos habituales que siempre acaban transando a última hora

bueno en la propuesta que hacen ustedes yo creo que se hacen una serie de afirmaciones

tal y como yo la interpreto es decir se dice que se incumple la progresividad y entonces

recargar el irpf l sociedades patrimonio que paguen los ricos lo siempre no y el impuestos de sucesiones y donaciones lo mismo que paguen los ricos

muy progresivo que depende aquí como saben de las diputaciones forales que son las que marcan los tipos impositivos un ejemplo

un trabajador soltero sin hijos de treinta y seis años que cobre catorce pagas si cobra mil quinientos euros que por cierto es el salario más habitual según los datos de ine si cobra mil quinientos euros paga cuatro mil doscientos de irpf

estoy redondeando paga ocho mil seiscientos de irpf

al mes paga treinta y dos mil seiscientos de irpf

de irpf es decir el primer ejemplo el del sueldo medio de euskadi

se ha multiplicado el salario el esfuerzo fiscal respecto de ese ejemplo al último hasta

paga cuatro mil doscientos euros

decir se acaba yo creo que esto demuestra vamos los ejemplos que además pone la diputación foral en sus propias webs yo creo que vamos

no es progresivo esto otro aspecto interesante es que siempre hacen referencia a lo de siempre no que paguen las personas con mayor capacidad económica tal antes decían directamente los ricos ahora es personas con más capacidad económica pero y qué es más capacidad económica cobrar treinta mil euros

según los datos de la agencia tributaria uno de cada doscientos trabajadores cobra por encima de ciento cincuenta mil al año

no es en absoluto tampoco la gran mayoría ni sobre todo parece suficiente como para financiar esos gastos que ustedes

hablando del impuesto de patrimonio se habla textualmente de equiparar la presión fiscal de la comunidad autónoma de euskadi con la unión europea hombre

es precisamente a suprimir el impuesto de patrimonio muchos países de la unión europea no lo han tenido nunca nunca ni italia ni grecia ni portugal ni hungría ni reino unido otros lo han ido eliminando austria en el noventa y tres

y en dos mil uno polonia y holanda irlanda luxemburgo y finlandia en dos mil seis suecia dos mil siete es decir en este momento en la actualidad no unión europea

que declara o que tiene el impuesto de patrimonio son noruega y suiza

que pongamos el modelo impositivo de suiza pues hombre no lo sé el impuesto de sucesiones pues mire el impuesto de sucesiones

pero en la mayoría de los países pues tampoco existe y si quiere otro dato pues también le digo en españa en dos mil dieciséis se recaudó por este impuesto de sucesiones

que es lo mismo proporcionalmente al pib que recaudó finlandia

o sea ya está el impuesto yo lo que no entiendo es de qué equiparación hablan porque ya está demasiado equiparado incluso un poquito por encima en el impuesto de sociedades me fijo solo en el impuesto

es un impuesto en este caso sobre las ganancias empresariales bueno

el general veinticuatro en territorio común veinticinco no sé qué dice empresas con mayor capacidad económica yo creo que esto es un poco la retahíla típica no las grandes empresas que por cierto dicen grandes corporaciones

lo de corporaciones eso es un deje de la mala traducción respecto del inglés qué aumentar los impuestos a las empresas para que ya se acabe con la actividad económica y por tanto ciertamente se acabe con la recaudación que pueda de sufragar el gasto público y el gasto social pues

en absoluto no votaremos absolutamente que no en consecuencia esta iniciativa y otras que suelen traer como una que han propuesto también sobre creación de un fondo extraordinario para los ayuntamientos

bancada sur bancada norte a ver no sé a ver quién es

cuida más a los suyos como dicen ustedes más cool más nacionalista a veces

más evidentemente no la compartí en absoluto pero me pareció una propuesta

la que presentó hace no mucho el señor soto en este parlamento originalmente la presentó en el pleno del día doce de noviembre y fue un debate que como siempre sus socios de al lado les acabaron canibalizando porque al final lo que quedó de ese pleno

a tumbar definitivamente el régimen del setenta y ocho y tal eso fue lo que quedó a aquel debate que insisto

pero vamos sí que le reconozco que hizo un trabajo dentro de lo que es su punto de vista pues un poco más serio pero vamos en absoluto

que esta iniciativa que lo único que busca es simplemente que no solo la mayoría del parlamento si no

no sé si para luego sacar un poco la cara del victimismo de no

es una cosa muy seria hay que hacer una reforma con papeles ya el penúltimo dato que le doy

pero es que tiene que contar toda la película y toda la película es que en españa incluyendo la comunidad autónoma del país vasco las empresas se hacen cargo de una serie de cargas de una serie de pagos

con lo cual si nosotros añadimos eso al gasto que ya supone el tipo del impuesto de sociedades pues la verdad es que aquí

con lo cual yo creo que la propuesta en absoluto

de nuestro voto favorable en cuanto a la transacción pues hombre las transaccionales tampoco y luego la del gobierno vamos la del grupo que apoya al gobierno yo una cosa simplemente eh le leo

es que el parlamento vasco insta a las instituciones competentes de los territorios históricos a que desarrollen y culminen compartiendo los resultados en los órganos de relación establecidos

de los resultados de las reformas aprobadas en dos mil quince y dos mil dieciocho incorporando en este análisis los elementos derivados de las consecuencias económicas de la pandemia de la covid diecinueve

y permitan la obtención de conclusiones útiles para los objetivos de la reflexión he tenido que respirar porque no había un punto no o sea les resumo les sintetizo vamos a ver qué pasa

la propuesta pero bueno nosotros en esta tampoco votaremos a favor nos abstendremos no solo porque es difícil de entender sino porque hombre tampoco cualquier estudio

mila esker legebiltzarburu andrea eta igual amaieratik hasiko naiz porque el señor gordillo aquí nos ha dado una clase de todo lo que no hay que hacer pero no ha dicho lo que hay que hacer

a las consecuencias de esta crisis pero no nos está diciendo cómo vamos a aumentar los ingresos tan necesarios no por lo tanto bueno si en la réplica me podría

pero al menos hemos traído una propuesta y decía es verdad que la progresividad en el irpf pues bueno está ahí pero

bastante importante y de hecho en la propuesta que hemos presentado en las diferentes juntas generales con la tasa covid así

un incremento sobre el tipo impositivo pero de las aquellas rentas

euros vuelvo a repetir y a subrayar eh exento

vale eso por un lado y sobre el impuesto de patrimonio

pero sí que es verdad en el impuesto de sociedades ahí sí que tenemos muchísimo margen

que las empresas que durante la crisis han aumentado sus beneficios porque las ha habido depende del sector en el que operan puedan aportar más y nos parece algo que es lógico que es el justo y que es de sentido común pero también con una excepción hasta los trescientos mil euros de beneficio eh ojo

que aporten es verdad que no va a suponer esto una cantidad ingente de dinero para nuestras arcas pero yo creo y considero que todos y todas estaremos de acuerdo que todo lo que ingrese en las arcas públicas bienvenido sea y hay gente como he dicho que lo puede hacer

plantean este tipo de cuestiones y de subidas también para aquellas personas y aquellas empresas que han obtenido beneficios a lo largo de esta crisis

de los apuntes de la réplica bueno simplemente voy a intentar resumirlo brevemente se decía eso que no es el momento decían las representantes de

y que es necesario un debate sosegado para una reforma fiscal ya pero es que estamos en plena pandemia es que el endeudamiento de mil setecientos millónes de euros lo estamos haciendo ahora es que el señor azpiazu ha dicho que el año que viene nos vamos a endeudar aún más entonces si no es el momento ahora cuándo es

semejante agujero tenemos que aportar también quienes actualmente aportamos a las arcas públicas y además es que aluden a la necesaria revisión de la reforma fiscal del dos mil catorce que esa sí que tuvo cierta profundidad y luego la de dos mil dieciocho que fueron unos pequeños retoques de la mano del partido popular para la aprobación de los presupuestos

pero es que llevan dos años con esta excusa llevan en las juntas generales dos años con la excusa de la revisión de dicha reforma laboral sobre todo como digo de la que se hizo en profundidad en dos mil catorce

hay que ponerse las pilas y es que además no entiendo muy bien porque y agradezco el reconocimiento que ha hecho la señora berrojalbiz de intento de transaccionar y de llegar a un acuerdo

ustedes decían lo contrario a lo que hoy han estado aquí sosteniendo decían ahora no es el momento no es necesaria una reforma fiscal porque esto entre otras cuestiones el incremento de la presión fiscal dificulta la salida de la crisis

que nos habían propuesto es el parlamento declara que se necesita una reforma fiscal profunda para lograr una política fiscal más progresiva y equitativa que acompañe a la política de endeudamiento

si en su programa de gobierno si en su programa de gobierno en el sexto de los compromisos tienen recogido la necesidad

diferentes posiciones que aquí se han mantenido decía no que

entonces por qué está el señor azpiazu el consejero de economía y hacienda diciendo que

si no eran austeros por qué el señor azpiazu está diciendo que se ha puesto fin a la época de la austeridad

es que son todo contradicciones de verdad lo que hoy estamos aquí

se me agota el tiempo es verdad que en nafarroa no hemos podido arrancar todo lo que hubiesemos querido pero por lo menos un compromiso de reforma fiscal para el dos mil veintiuno que dos mil veintiuno es ya eh dentro de dieciséis días y ustedes están diciendo que no es el momento pero bueno en nafarroa hemos conseguido ese

se habla también de los presupuestos generales del estado y como decía se comentaba aquí y se afirmaba que el incremento de la presión fiscal dificulta la salida de la crisis pero yo ahora voy a devolver la pregunta a ustedes tanto al partido nacionalista vasco como al partido socialista

ustedes han votado de manera favorable y ustedes han presentado en su proyecto de presupuestos generales del estado

modificaciones al irpf a las optimi o a los dividendos de la fiscalidad de los dividendos de las sociedades

entre la página ciento setenta y cuatro a berrehun eta zazpi eskerrik asko por lo tanto por qué en madrid sí y por qué

buenas otra vez no es el momento suele ser siempre

tres años en dos mil dieciocho se acordaron los presupuestos con el partido popular y la base de la negociación y del acuerdo presupuestario tuvo que ver con una reforma fiscal

supongo que claro la dirección de la reforma fiscal que planteaba el partido popular y la que podemos plantear

oportuno hacer un cambio en términos fiscales porque a la vez que al partido popular sí se le sí se le tramitaba esa reforma fiscal a nosotros aquí se nos decía una y otra vez que no era el momento

corresponde hacer reformas fiscales en los términos en los que nosotros y nosotras lo planteamos

ordinario en el que sí que se va a poder abordar esta cuestión en los términos en los que nosotros y nosotras lo planteamos y no en los que el partido popular o ciudadanos lo hace

al olentzero fruto del debate monográfico de ayer para carta al olentzero la previsible lista de proyectos que se enviará

que nosotros no conocemos han contactado con el gobierno vasco para fijarlos presupuestos austeros que los del dos mil veinte no lo fueron porque se acordó

presupuestos austeros o no lo eran perdón en vista de nuestro acuerdo lo son pero en lo que se refiere a las partidas acordadas con elkarrekin podemos ahí sí que se ha aplicado la austeridad se han aplicado o sea se han ejecutado tan pocas usted decía que el juez se nos pasó

preguntas que formulamos por escrito en relación con la ejecución e inejecución de las partidas en nuestro acuerdo ya le traeremos aquí no se preocupe

las cifras exactas del cumplimiento de los acuerdos presupuestarios del dos mil veinte

porque son francamente preocupantes en relación con la disposición del gobierno vasco en el cumplimiento de un acuerdo presupuestario en fin le voy a poner algunos ejemplos

para combatir la violencia machista prácticamente no se ha aplicado o no se ha ejecutado nada se ha derivado al dos mil veintiuno muchas de esas partidas

se han derivado para hacer frente al covid esa es la respuesta

con la violencia machista en políticas medioambientales de cuarenta y cinco millónes presupuestados

ejecutados hay cuarenta y cinco mil euros de un estudio de jaizkibel se han puesto en marcha algunas convocatorias de subvenciones que ni siquiera se han terminado de cerrar en empleo y desarrollo económico aparte del fondo incrustado en en el programa

han derivado en dos empresas en ayudar a dos empresas únicamente del resto de partidas acordadas nada se ha ejecutado no sé ya le traeremos aquí el documento

disgregado para que en fin matice usted

de dos mil veinte se refiere dice que por qué no en españa aplicamos lo que aquí décimos mire en españa nosotros

somos el partido minoritario del gobierno de coalición nosotros marcamos un horizonte

y allí que es una reforma integral de la política fiscal tanto en el régimen común como aquí

y las reformas fiscales que se mencionaban que se han realizado o los cambios fiscales que se han realizado a nivel del régimen común han sido fruto sí del impulso de unidas podemos a nivel estatal porque si desde luego aplicamos la lógica

a nivel estatal los pocos que se han hecho ha sido gracias al impulso de unidas podemos aquí se hubiese hecho alguno si el partido socialista hubiese hecho también ese ejercicio

al partido nacionalista vasco allí donde pudiese haber aplicado reformas fiscales pero desde luego no es su apuesta ni en euskadi

el país vasco aplica el principio de progresividad y que en relación con el régimen común desde luego no es un lugar que atraiga en términos competitivos a empresas por sus condiciones fiscales pues todos los observatorios en relación con la competitividad fiscal a nivel estatal marcan que

son los territorios donde más facilidades ofrecen para la instalación

para que se instalen empresas por el régimen fiscal

cuándo se habla de competitividad fiscal de lo que estamos hablando que es un eufemismo para decir que se les poco se les cobra poco por los beneficios que logran

en relación con esta cuestión lo dejan meridianamente claro bizkaia araba y después madrid y si para madrid ha sido necesaria una armonización fiscal que se va a aplicar para todo el régimen común y todo el estado

del estado por qué no también aquí un principio de armonización fiscal en el tipo mínimo del impuesto de sociedades

o como mínimo se pague el mismo tipo de impuesto de sociedades como mínimo el mismo eskerrik asko

señor estarrona efectivamente esta crisis no solo se puede pagar con deuda no solo la pueden pagar las futuras generaciones estamos de acuerdo también vamos a tener que hacer una reflexión de qué parte de esta crisis tenemos nosotros que asumir y entrará en juego la reforma fiscal

queremos que la fiscalidad vasca tienda a la convergencia fiscal en europa y que permita adaptarse a la economía y a los retos emergentes incluyendo los criterios también medioambientales y los objetivos de la agenda dos mil treinta pero el consejo de la unión europea también ha estimado que los aumentos en la imposición directa disminuyen las posibilidades efectivas

en estos momentos generaría empobrecimiento y podría poner en peligro la demanda que es lo contrario a lo que queremos conseguir ahora

se orientó a la consecución de un sistema fiscal más justo progresivo y eficiente por ello además de incidir en la modificación de determinadas figuras tributarias también se adoptaron medidas de lucha contra el fraude fiscal y la ilusión

interinstitucional de lucha contra el fraude que entre otras medidas ha impulsado

en la lucha contra el fraude fiscal los socialistas vascos

nuestro compromiso con una fiscalidad justa y progresiva es claro y estamos ya en la revisión de las reformas fiscales del dos mil trece y dos mil dieciocho trabajando por tanto ya en una propuesta en una nueva propuesta fiscal sí es verdad que estamos ante un presupuesto expansivo también estamos ante una serie de medidas directas que están conformando como decía antes esa red de seguridad estamos ante una concertación de nuevos impuestos y también se han aprobado diferentes modificaciones tributarias todo ello hace que tengamos un debate más sosegado que seamos capaces de evaluar cómo van a impactar estas medidas en la economía y que cuando estemos en otro momento de relanzamiento

el momento creciente sí que podamos abordar una reforma fiscal porque como saben las reformas fiscales

en crisis es cuando no se recomienda tocar la fiscalidad hay que en ese sentido ser también prudentes y tener en cuenta que estamos hablando de una reforma fiscal profunda estructural

alcance no se puede tocar la fiscalidad para tratar de arreglar todo la fiscalidad es un instrumento fundamental y mucho más importante que todo eso

que coincidimos en los principios y en el diagnóstico pero sí es verdad que los tiempos bueno pues son diferentes porque entendemos que también hay que dar paso

por último también quiero recordar ya que me queda un poco de tiempo que euskadi

quiero recordar que estamos en un cuarenta y nueve por ciento de tipo máximo cuando comunidades limítrofes u otro tipo de comunidades como madrid está en el cuarenta y tres coma cinco castilla la mancha cuarenta y cinco aragón berrogeita zazpi koma bost bueno

cuando hablamos tanto se suscita tanto el debate de tributar también las rentas altas en todo caso sí quiero agradecer el esfuerzo que ha demostrado señor estarrona

pero confío que en el próximo debate que tengamos que tendremos muchos y abordemos esa reforma fiscal

miren si hoy estamos donde estamos si somos un país moderno y avanzado es gracias al esfuerzo y al trabajo desarrollados tenemos

tenemos que seguir progresando y reconstruyendo lo que esta terrible pandemia está destruyendo pero gracias a lo que el partido nacionalista vasco durante años y años ha hecho tenemos estas cotas de autogobierno económico financiero unas cuentas saneadas con margen de endeudamiento con capacidad de reasignar recursos y un relevante músculo en sanidad

y todo ello ha servido para cumplir con nuestro compromiso de presentar hoy unos presupuestos para el dos mil veintiuno valientes expansivos y sin recortes en salud educación y políticas sociales si bien debemos seguir trabajando para fortalecer nuestro sistema y desarrollarlo porque el esfuerzo bien merece la pena porque trabajamos por el bien común de nuestra sociedad

en estos últimos meses tan complicados esfuerzo compromiso y solidaridad debemos ir por la línea de la lucha coordinada con las instituciones forales en contra del fraude fiscal que esa reforma fiscal pueda ser revisada una vez veamos los resultados en la reactivación económica y social

del dos mil veintiuno que hoy mismo se han presentado en este parlamento presupuestos valientes y sin recortes sí reforma fiscal también pero no ahora y sí lo décimos señor estarrona en nuestro programa de gobierno pero hay que leer todo lo que dice el programa

nosotros cumplimos nuestros compromisos porque obviamente dice que no hemos hecho una reforma fiscal y que la covid es una excusa me va a permitir a mí usted decirle que excusa del covid pues creo que excusa no es creo que la covid es algo que está paralizando el mundo al menos la reforma fiscal también soto jauna bi mila hogeiko aurrekontuei akordioari buruzkoa

pero la pandemia obviamente ha alterado las prioridades como usted puede entender respecto a las partidas pactadas

y porque has citado ciertas de ellas como salud y educación por ejemplo pues se ha invertido más de lo pactado o en temas de igualdad

para visibilizar a la mujer o la casa de las mujeres por ejemplo el confinamiento

por eso nos hemos comprometido y así lo hemos dicho por escrito a incluir lo no ejecutado en los presupuestos de dos mil veintiuno

cada vez que se plantea un problema de crisis evidentemente de cuadratura de cuentas siempre hay dos soluciones que plantean desde

que por cierto el otro día se abstuvieron ustedes cuando el gobierno propuso un aumento de la deuda una cosa

aunque bueno las incongruencias ya se las ha también recordado la señora berrojalbiz del pnv

como este por ejemplo los aumentos de impuestos tienen que ser cualquier

por el efecto que puede tener precisamente contrario a lo que implica que es el aumento de la recaudación eso yo entiendo que lo controla usted que lo sabe usted me dice no es que me tiene aporte soluciones ya le doy yo soluciones las soluciones son precisamente la bajada de impuestos

y sobre todo mejorar la eficiencia del sistema recaudatorio y mejorar la eficiencia de la administración

esa es la vía que hay que seguir en cuanto a la competitividad que antes decía de ciertos territorios hombre

por cierto nosotros gobernamos en estos dos últimos esto tiene que ver también con otras cuestiones como puede ser la seguridad jurídica como puede ser la facilidad para abrir un determinado negocio etcétera es que eso es muy importante mire lo que ha pasado en cataluña mire lo que ha pasado en cataluña

es que ustedes demonizan siempre a las empresas pero

pero se acuerdan de ellas cuando hay que cobrarles impuestos quieren subirles los impuestos ahora a los hosteleros pues hombre yo la verdad es que sencillamente

incongruente y creo que es totalmente contrario a lo que se debe buscar que es una eficiencia del sistema fiscal una mayor eficiencia del sistema fiscal y sobre todo una mayor eficiencia de lo que es el gasto en la administración

los pactos cruzados que vivimos también en esta cámara son un poco complejos a veces

luego ustedes con podemos y bildu suelen votar en conjunto pero luego también ahora en madrid resulta que están intentando sustituir

en ese proceso un poco generalizado de blanqueamiento que han empezado ahora es un poco complicado a veces seguirles pero bueno los que están en el poder ahora aquí les han dicho que

bueno el día que se plantee una reforma fiscal yo creo que habrá que hacerla vamos y nosotros estaremos ahí para analizarlo y vigilarlo cualquier proceso de reforma que se haga de la fiscalidad tiene que hacerse con papeles con estudios y con análisis insisto es que

cualquier agencia o cualquier institución el international bureau of fiscal

con sede en ámsterdam que es uno de los más prestigiosos que hay o

es que precisamente de lo que se encarga es de visibilizar esto que es lo que le he dicho antes es que vamos a ver es un poquito inferior el impuesto de sociedades ciertamente aquí pero eso tiene que ver porque el empresario aquí

que no asumen los empresarios en esos países hay que analizar el modelo en su conjunto hay que analizar el modelo en el conjunto de las prestaciones sociales la competitividad efectivamente cuáles son los servicios que se plantean

en el territorio histórico de bizkaia pues no evidentemente yo

esas son las recetas aumentar la competitividad mejorar la economía precisamente para que se puedan recaudar más impuestos

y con esto se hace que se pueda efectivamente financiar

kanpotik etorri direnei agurtzea eta eskerrak ematea federación de asociaciones de inmigrantes de bizkaia representantes también del del colectivo de mujeres inmigrantes

emigrados sin fronteras ongi etorri errefuxiatuak y

entre otros y otras aitortu behar dut jatorriz aurkeztu genuen

cuando tratamos este tipo de temas siento y lo he dicho alguna vez

otros porque si bien hoy lo que estamos haciendo es dar un pequeño paso adelante las personas que me han precedido

político y también las personas de la sociedad civil que llevan toda la vida luchando y dando lo mejor de sí para avanzar en derechos para las personas en este caso migrantes para las personas pues creo que el listón está

muy muy alto pertsonak esaten dudanean

la garantía de derechos y la garantía de una euskadi del futuro en condiciones

por nacimiento es una cuestión circunstancial pero la opción de ser una sociedad acogedora es la opción que euskadi que los vascos y las vascas

y para el futuro decía eduardo galeano que desde siempre las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío año

y los salmones y las truchas en busca de sus ríos ellos

miles de lenguas por los libres caminos del aire y del agua

los caminos del éxodo humano y eso que podríamos decir que prácticamente es un hecho innato del ser humano todo ello a pesar de que el artículo número catorce de la declaración de los derechos humanos asiente el derecho a la libre

de las personas es una pena también es verdad que los consiguientes pactos internacionales por las migraciones restringieron y limitaron ese derecho

de los estados esaten nuen lehen pertsonei buruz hitz egiten ari garela hablamos de sujetos de derechos derechos formales pero no siempre derechos

mandatua hay que hacerse una pregunta siempre con la migración zergatik etortzen dira europara tiene algo que ver con nuestro desarrollo con lo que externalizamos de nuestro modelo de desarrollo con la desposesión de las tierras que hacen empresas que tienen su sede fiscal

territorios tienen algo que ver con el cambio climático

o con las crisis económicas porque sí la inmensa mayoría es por causas

creo que dando todas las mañanas toda la mañana cifras sobre esa desigualdad tan radical que tiene nuestro mundo y por qué vías vienen pues no viajan como lo solemos hacer nosotros por avión viajan vienen se trasladan

por las únicas vías que les dejamos con la política de militarización de las fronteras vienen por el mar por vías inseguras en los últimos años en los últimos cinco años más de diez mil personas más de diez mil personas han muerto

todas y cada una de esas muertes evitables y por no hablar de que además esa militarización de las fronteras que hace la unión europea y que además tiene contratada a esos grandes gendarmes del mar y de la migración

de libia eso es la vía ofreciendo además del chantaje histórico también al que nos somete la dictadura

poco esta práctica institucional hemos asistido en los últimos años al aumento de un enorme de un discurso del odio de la extrema derecha de un fast food ideológico que por desgracia ha sido comprado y está siendo comprado

europeo una extrema derecha que intenta enfrentar personas y que una vez más vuelve a demostrar su fortaleza con los débiles y su debilidad fuertes por tanto y tal y como recoge el acuerdo que hemos firmado entre los cuatro grupos parlamentarios nuestro más absoluto rechazo a estos discursos estigmatizadores me parece importante además que como parlamento combatamos estas narrativas

que en el marco de la unión europea se da en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas y de las personas migrantes

con la reducción de medios económicos humanos y materiales necesarios en el salvamento marítimo humanitario por ejemplo nuestro grupo parlamentario en el parlamento europeo su propuesta alternativa a la política migratoria europea propone

que es justamente todo lo contrario a la política de militarización de

el estado español ahí sí que tiene algo que aportar en materia que es el único estado

marítimo de carácter público y además cuenta con una fuerte sociedad civil que

está trabajando para salvar a las personas que tienen riesgo de ahogarse en el

además en nuestro acuerdo lo que estamos señalando es que la unión europea lejos de lo que está haciendo tiene el deber

tiene que ampliar la política de visados de asilo y de protección

la vida y la integridad de las personas migradas y refugiadas en su tránsito migratorio akordioarekin jarraitzen ezinbestekoa da

harrerarekin lotuta que el cumplimiento de la mayoría del acceso a la mayoría de los derechos se hace a través del acceso al padrón como aprobamos también en la proposición no de ley del año dos mil diecinueve pero todavía eso no se ha cumplido ni el papel de coordinación

de nuestros territorios y además el acceso al padrón como decía cristina garcía de andoin de ongi etorri errefuxiatuak en un reciente artículo

sin padrón no existimos y es la llave para acceder a cualquier derecho ciudadano

para los ayuntamientos es una obligación empadronar y ese es el mandato también que

en el día de hoy porque con el padrón además se garantiza el acceso universal a todo tipo de servicios y además se facilita

es especialmente más grave y para las personas migrantes y mujeres aún más el padrón es uno de los elementos principales para romper el círculo de la precariedad y por tanto además también lo que décimos y lo dijimos en dos mil diecinueve es fundamental que desde el gobierno vasco se lidere la apuesta por el acceso universal al conjunto de servicios públicos y derechos como el de salud y educación

entre el estado y las comunidades autónomas en breve el sistema de acogida a solicitantes de protección

por las comunidades autónomas y pensamos y por eso también en este caso complemento el acuerdo

escrivá a coordinarse que nadie se quede fuera

la gestión de los derechos de miles y de miles de personas por tanto seguir desarrollando medidas que sirvan para avanzar

o que transitan por euskadi pero además sí que me gustaría además de celebrar el acuerdo

de dos temas más que creo que son fundamentales que las cuatro fuerzas políticas que firmamos este acuerdo las trabajemos más allá de este parlamento

en ese sentido desde unidas podemos en el congreso de los diputados presentamos hace unas semanas meses diría ya una proposición no de ley en el congreso de los diputados para la regularización de las seiscientos mil personas que viven con nosotros y con nosotras en el estado español

del ataque entre nosotros pero sí de la reflexión intentemos ponernos de acuerdo porque si estamos de acuerdo con lo que dice la literalidad del pacto vasco por las migraciones tenemos que apostar por la regularización de las personas que viven con nosotros por tanto

grande con esto y por último el reconocimiento

civil a los distintos agentes que han trabajado históricamente en el país vasco por la solidaridad con las personas migrantes refugiadas y también con las personas apátridas que también viven muchos y muchas entre nosotros a ongi etorri errefuxiatuak a zaporeak a irungo harrera sarea a la federación de migrantes de bizkaia a la coordinadora de ong de euskadi a emigrados sin fronteras a cáritas definitivamente a todas las organizaciones que tenemos en euskadi a nivel territorial y a nivel local

toda la vida para luchar por los derechos de estas personas y por tanto la mejor manera de ese agradecimiento que es que estos cuatro grupos parlamentarios que el gobierno vasco y el conjunto de las instituciones cumplan esta proposición no de ley y el conjunto también de las normativas aprobadas en euskadi en esta materia y por eso también hemos incluido algo que

la ley vasca de cooperación al desarrollo y la ley de la carta de justicia y solidaridad con los países empobrecidos eskerrik asko a todos y a todas y también gracias por el acuerdo al que hemos llegado

gracias presidenta consejero consejera señorías buenos días y también a los invitados que nos acompañan bueno quiero decir que yo pediré

de los puntos de la enmienda de transacción

votaremos que sí a algunos puntos y nos abstendremos en otros

hay que seguir avanzando en las políticas de ayuda a las personas

y tanto la unión europea sus instituciones como los estados miembros tienen todavía

que realizar tienen muchas tareas pendientes en relación con esta cuestión por eso la preocupación principal de nuestro grupo sigue siendo

en otros debates y en otras intervenciones sigue siendo

en este caso la unión europea sus estados y las instituciones

tantas personas que pueden intervenir en esta cuestión del tratamiento de la política de refugiados de

coordinada o una cuestión conjunta dentro del ámbito europeo además en el marco europeo de respeto de los derechos humanos y en esa posibilidad

de asumir labores coordinadas de protección de acogida de las personas que se van que huyen que se

su ilusión en otros sitios por diferentes causas está claro que todo lo

con dolor y con sufrimiento no el drama del mediterráneo

complicada situación de canarias tantas otras cuestiones que afectan a las fronteras que afectan a los puntos de acceso que afectan a los países limítrofes

por el consejo por la comisión por el parlamento europeo desde luego con una capacidad mayor y permanente de una mejor protección de las personas

referirnos sin más no también con capacidad de lucha contra

provocando dentro de las personas migrantes de los que buscan refugio amparo asilo pues tantas víctimas no entre todas esas personas es decir toda esa criminalidad esa mafia esa política

que también tiene que buscar una y ser neutralizada

y decididamente también entroncando todo esto todas estas políticas con la labor de cooperación al desarrollo orientadas a esos países con necesidades

con esas misiones de pacificación a países con conflictos eso también en colaboración los estados o la propia unión europea con otras instituciones como naciones unidas

cuestiones pendientes en todos esos vectores en todos esos ámbitos

conjuntos unidos la unión europea sus estados y las instituciones que

común es decir no pasa lo mismo en álava que en burgos seguramente

en relación con estas cuestiones o que en el sur de francia pues probablemente y tenemos que compartir todas esas cuestiones de una manera

no hacer políticas o diseñar políticas exclusivas o propias con marcado acento no porque tienen que

eso sería lo necesario con políticas potentes activas y coordinadas en el ámbito y en el marco

nosotros eso discrepamos un tanto de eso del marco vasco de acogida el marco no es el marco europeo es un marco

tendremos que hacer porque tendremos que colaborar pero tendremos que formar parte de un modelo europeo de acogida no el marco de actuación donde los estados sus instituciones la unión europea

integradores de la unión europea de su espacio no también en estas cuestiones y en estas políticas

laborales o en tantas otras políticas o las agrarias sino que tenemos que hablar también aquí en un marco de integración europeo y en eso es en lo que

y porque nosotros también somos dependientes en relación con las cuestiones y con los trabajos o con las actuaciones que nos toque realizar también en las políticas

de esos de esos otros marcos y de esas otras decisiones que se toman no o sea que en ese sentido esa labor tiene que estar coordinada nosotros entendíamos que podíamos hacer una enmienda

lo que el gobierno vasco plantee como necesidades y los instrumentos que ve en ese marco de actuación cuáles son o cuáles serían o cuáles hay que propiciar y en cuáles está trabajando porque también sabemos que el gobierno también trabaja en esos marcos ya se nos ha explicado

en coordinación con el resto de las administraciones competentes en el marco de las políticas de la unión europea

de totalidad nosotros como decía antes los acontecimientos

de solidaridad entre algunos estados miembros por la negativa categórica

de ellos a aceptar el sistema de asignación propuesto por la comisión como decía antes los naufragios en el mar mediterráneo los campamentos de refugiados lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en muchos de ellos en muchos campos de refugiados como el de moria o lo que pasa con el acuerdo de turquía

son cuestiones que forman parte de algo que no funciona bien no nosotros entendemos también y vemos con ilusión no el objetivo de hacer frente a estas dificultades y deficiencias por parte de la unión europea no la comisión europea presentó el veintitrés

recientemente un nuevo pacto sobre migración y asilo migratorio no encontrar un consenso a nivel europeo para el nuevo enfoque para un pacto migratorio que es que es lo que constituye una de las prioridades de la presidencia de la señora der leyen no pues

por las que hay que profundizar y que nosotros queremos integrarnos y entender como necesarias en esa coordinación

más duradero no el sistema ha introducido en verano de dos mil quince a propuesta de

deseado al no ser respetado por muchos estados miembros por hungría polonia o muy poco respetado por otros como austria o la república checa pues ahí están las dificultades que tenemos que ser capaces de superar y la solidaridad

menos restrictivo menos flexible que se está haciendo ahora por la parte de la unión europea no obstante a diferencia de los anteriores el nuevo pacto para el asilo y la migración no prevé el sistema de reparto de inmigrantes con cuotas obligatorias por países

de colaboración y responsabilidad compartida pues vamos a ver si eso es un elemento un punto de encuentro donde todas las instituciones podamos integrarnos de una manera más eficaz que lo

pediremos si nadie se opone votación separada de son seis puntos votaremos a favor del primer punto en relación con bueno rechazar la preocupación por la proliferación de discursos que criminalizan

hay que hacerlo en cualquier caso estamos hablando de personas de derechos humanos de personas que sufren o sea que el que utilice eso pues para criminalizar para acusar injustamente pues bueno tiene que ser desde luego denunciado y

nosotros sí que vemos que solicitar el impulso de políticas en el marco de los derechos humanos tiene ya lo decía antes

tenemos que hacerlo conjuntamente también votaremos a favor de la número tres por instar al gobierno a avanzar en la coordinación interinstitucional con el estado para atención a la acogida a las personas es básico la coordinación lo decíamos o sea que en ese sentido pues a nivel europeo a nivel español la coordinación es el elemento fundamental votaremos a favor y votaremos a favor de la número seis

en relación con las dos cuestiones que plantea cómo reconocer la labor de los agentes de la sociedad civil que prestan su apoyo pues desde luego es incomiable pues el hecho de que haya personas que desde luego su tiempo y

lo utilicen así de esa manera yo creo que eso es un valor que tenemos y el hecho de desarrollar la normativa vasca de cooperación al desarrollo nosotros para nosotros es un pilar básico la cooperación al desarrollo

de la situación que vivimos las otras cuestiones entendemos que forman parte de ese

modelos europeos modelos integrados más que esfuerzos puramente declarativos

y en el tema de conformar grupos de personas expertas en materia de extranjería pues sí pero a nivel europeo

seguir formando grupúsculos no nosotros entendemos que son esfuerzos que hay que hacerlos

del estado muchas gracias eskerrik asko barrio jauna mixtoa martínez andrea

buenos días a todos y a todas desde vox nos alegramos de que este debate llegue en estos momentos todos sabemos que las islas canarias están desbordadas absolutamente incapaces de dar cobertura a una verdadera avalancha de personas que llegan a sus costas convirtiendo el archipiélago en el nuevo centro de inmigración masivo

señores parlamentarios para debatir sobre inmigración hay dos posibilidades o somos realistas y tratamos de tener una discusión fructífera pegada al mundo realmente existente o nos vamos por peteneras por principios utópicos muy bellos escritos en un documento o en una ley pero que no tienen en cuenta las condiciones materiales plurales

migratoria por otro lado es curioso pero he leído todas las propuestas y solo he visto hablar de derechos de la inmigración que por supuesto está muy bien tienen derechos pero qué pasa con los deberes y las obligaciones acaso esto solamente existe para el autóctono vasco durante la preparación de este punto he leído conceptos como ciudadanía universal

no se han dado cuenta de que esta ciudadanía universal no se da en el mundo acaso las vacunas se repartirán según el criterio de un hombre una vacuna o por el contrario son los grandes bloques políticos los que negocian buscando el bien

nacionales qué es para ustedes ciudadanía universal de qué estamos hablando

esa ciudadanía universal cuando además los vascos nos peleamos por ser los primeros en recibir más y mejores vacunas sin tener en cuenta al resto no ya de españa sino del mundo todo lo que sea diseñar planes o tratar fenómenos desde postulados falsos

solo sirve para calmar las conciencias de quienes desde el primer mundo hacen política pero no ayudan en absolutamente nada a las personas que viven en ese otro lugar del mismo planeta pero lejos del bienestar de occidente quién de los presentes se atreve a ir a lesbos y tener la desfachatez de mirar a los ojos a los allí hacinados

universal y de la bondad de europa lo que se me dirá es que otro modelo es posible uno que fomente la diversidad cultural y la integración entre toda la sociedad

deseos con realidad para muestra un botón cáritas denuncia que está desbordada los índices de paro están por las nubes la economía no genera empleo y mucho menos de calidad hace no tanto discutieron sobre el desastre del empleo juvenil en nuestra región

humano de españa con este panorama con esta realidad social y política económica cabe hablar de acogidas y de integración feliz o por el contrario perpetuamos una condición absolutamente desigual

desde vox décimos basta ya basta de cinismo tomemos en serio ese fenómeno de la inmigración y hagamos política pegada al suelo sin mezclar ensoñaciones con realidad

bien dicen en la transaccional en el punto número seis con el cual estoy plenamente de acuerdo ayudemos a paliar en los países de origen

el odio lo inoculan ustedes en los que llegan visto que su esfuerzo por llegar aquí ha sido en vano y que llegan a un país que solo les ofrece más miseria que además se añade

gracias presidenta en primer lugar y en nombre del grupo socialista

y cómo no reconocer la enorme labor que desempeñan tanto en lo que a salvamento se refiere como en los campos de refugiados de personas refugiadas

en funcionamiento de redes de solidaridad y acogida tanto in situ como aquí en nuestro país así que gracias a todas esas personas por su generosidad y compromiso eskerrik asko

la consideración de que el hecho migratorio es un fenómeno estructural y consustancial a nuestra existencia que se ha convertido en una en este mundo globalizado que nos ha tocado vivir y que este hecho viene derivado fundamentalmente de las transformaciones tanto sociales como económicas como políticas que se están produciendo en todo el mundo y también es cierto que aunque en este siglo este siglo que ya va avanzando

socioeconómica hasta los conflictos bélicos tanto nuevos como los encallados esto significa que el fenómeno efectivamente se ha exacerbado y ha venido creciendo

martínez porque la historia de la humanidad es una historia de migraciones

lo dijimos y lo vamos a decir siempre no solamente cuando compartimos este tipo de iniciativas también lo décimos donde haya que decirlo la realidad que vivimos es que muchas personas mujeres hombres y niños de toda clase y condición

tienen que desplazarse de su casa de su entorno vital de la vida que han conocido hasta ahora buscando un futuro mejor más seguro y menos incierto y la realidad

y abandonar todo lo que tienen lo poco que tienen porque se ven obligados a huir para poder sobrevivir porque huyen de zonas de conflictos enquistados huyend de la guerra de la falta de libertad de la violencia la pobreza del hambre de la muerte y aunque desde el punto de vista humano

con una absoluta falta de perspectivas de futuro singularmente en contextos de conflicto y de violación de derechos humanos y asumimos también unos más que otros todo hay que decirlo

constituye un principio democrático una cuestión de orden ética y jurídica de cumplimiento del derecho

tenemos que diseñar y planificar una política común

e inmigración lo decía el señor barrio y coincido con él una política común

como siempre pasa lo mismo de siempre y es que la realidad

una respuesta ni necesaria ni mínimamente suficiente de manera que tenemos que volver a insistir en la necesidad urgente de incorporar a la agenda europea esos visados humanitarios que permitan un acceso seguro a los demandantes

tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de dignificar los centros de recepción a esas personas que ponen sus esperanzas de supervivencia

instituciones y obviamente tenemos que insistir y seguir insistiendo en el imperativo de definir los criterios y sistemas de distribución

mención el señor barrio entre los países europeos bajo principios de igualdad corresponsabilidad y solidaridad

hecho y de derecho y sobre todo también tenemos que insistir en que es imprescindible que reconozcamos

coincido plenamente con él que reconozcamos como digo el valor de la diversidad y que su integración

un desafío y una oportunidad para todos nosotros porque hay una realidad que es impepinable y es que todos aquellos países aquellas sociedades más prósperas

la diversidad como la herramienta más útil para conseguir esa sociedad igualitaria y equitativa que pretendemos para el futuro señorías

la igualdad entre otras cosas se basa en el respeto de la diversidad así que como decía aquel y usando una frase

está siendo manida pero es lo que quiero trasladarles o seremos diversos o no seremos hace

poco más de un año señorías efectivamente se debatió una proposición no de ley

elkarrekin podemos y en aquel momento concitó un acuerdo muy importante hoy afortunadamente hemos conseguido reeditar el mismo acuerdo incluso mejor mejorado lo hemos mejorado a la vista de las manifestaciones del representante del partido popular al que agradecemos obviamente su incorporación al acuerdo y por tanto

además hace dos meses también hace menos de dos meses cuando debatimos la proposición no de ley de bildu relativa a moria también llegamos a un acuerdo muy amplio y por lo tanto suyo que era previsible que hoy lo lográramos pero en cualquier caso es una cuestión

yo no voy a insistir en la literalidad del acuerdo porque a pesar de

de la iniciativa original porque en fin era un poco difícil de gestionar

nos permitía igual dispersarnos un poco yo creo que

es muchísimo más en fin asimilable y por lo tanto da mandatos mucho más concretos

yo creo que el acuerdo lo que hace es efectivamente recoger el espíritu

por la inmigración que no supone otra cosa que un compromiso compartido con la convivencia

plantea el desarrollo y diseño de un modelo integral de acogida y entre otras cosas reconoce efectivamente porque nosotros no somos una isla

en la coordinación interinstitucional con el gobierno de españa como no puede ser de otra manera y efectivamente habrá que realizar ese estudio y habrá que negociar entre los departamentos o en la comisión mixta de transferencias en su caso y atendiendo a la agenda

y yo creo que además en fin está bien esto de desarrollar el pacto el quinto plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía interculturalidad e inmigración dos mil dieciocho dos mil veinte pero efectivamente yo creo que en esta legislatura también tocará

extraer las conclusiones que sean para que como tal y como se prevé en el acuerdo de gobierno

y el partido nacionalista vasco se presente a lo largo de esta legislatura el sexto plan se desarrolle

en nuestra comunidad que están previstas en dicho acuerdo de gobierno

euskadi efectivamente no es una isla y tampoco es un receptor directo de un flujo migratorio directo pero la verdad es que

un sistema de servicios sociales que aguanta cualquier comparativa cualquier comparación tenemos también una muy amplísima red de organizaciones

de manera generalizada una ciudadanía comprometida y solidaria y con estos mimbres

y citas pues creo que no deberíamos tener tanto miedo a la inmigración porque la realidad

surgieron a partir de formas de mestizaje así que vamos a contaminarnos que está muy bien eso y luego

resistirme a parafrasear a gabriel celaya en aquel poema que cantaba paco ibañez

medio siglo sobre la tierra seguro que recordamos la diversidad señorías es un arma

cargada de futuro gracias eskerrik asko gallástegui andrea euzko abertzaleak

volver a manifestar nuestro profundo rechazo y preocupación

en todo el mundo de discursos destructores y racistas que criminalizan la migración ya lo hicimos en el acuerdo que conseguimos suscribir la mayoría

y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas

esta semana he tenido la oportunidad de leer una entrevista que le hacían a carlos martín beristain premio rené cassin de derechos humanos dos mil veinte y él

él decía que en muchas ocasiones cuando hablamos de conflicto sobre derechos humanos mucha gente en vez de preguntar oye qué opinas sobre esto

algunos y algunas se quedan en la retaguardia y prefieren simplemente posicionarse me recuerda a aquel famoso spot publicitario que decía error señora martínez error sigo con una frase que pude leer en esa misma entrevista

y sí muchos y muchas de esas personas migrantes que huyen de sus países no lo hacen por gusto

una cuestión de dignidad y las tenemos que acoger con cariño y respeto como decía la carta de presentación del pacto social para la migración ofrecer lo que desearíamos recibir y creo que en eso estamos todos y todas de acuerdo

para avanzar en la reflexión y análisis del marco legal que permita llegar al máximo de las competencias autonómicas en el ámbito de la inmigración extranjería y convivencia entendemos que ello favorecerá la acogida atención integración y protección de los derechos humanos

por otro lado seguir avanzando en el desarrollo de las medidas previstas en dicho plan de actuación y en el documento marco del gobierno vasco para orientar de forma compartida la respuesta social

a la crisis humanitaria que sufren las personas refugiadas en las fronteras europeas consideramos a su vez como he dicho anteriormente y así lo recogemos en nuestra transaccional que la acogida de personas migrantes y refugiadas en euskadi debe ser ejecutada dentro de un marco vasco de acogida de carácter en colaboración y con la participación de instituciones y agentes sociales en especial el foro para la integración y participación de la ciudadanía inmigrante en euskadi en pos de una acogida y atención digna e íntegra

la afirmación de la señora o la paráfrasis de la señora gallástegui quien no tenga cincuenta años sí que hemos escuchado en mi casa a paco ibáñez y hemos leído a por supuesto a gabriel celaya y algunas aclaraciones

por nuestra parte no hay ningún problema para la votación por puntos por supuesto

cuando intentamos traer el debate euskadi españa europa

europa tiene sus competencias hacemos referencia a esas competencias el estado tiene sus competencias que por cierto como lo decía la señora

en breve la competencia de la gestión del sistema de

va a pasar a ser gestionada además por una sentencia del tribunal supremo por las comunidades autónomas y por supuesto por tanto tenemos que desarrollar

la competencia en la gestión de fronteras en las que también desde el gobierno de españa y desde el congreso de los diputados hemos hecho nuestras propuestas como la que decía por supuesto también en otra competencia que en este caso es estatal también como es la de la regularización de las personas que viven con nosotros y nosotras que insisto que es una de las

materia y que gobiernos en otros momentos del partido popular y del partido socialista lo hicieron y que esperamos que con el impulso de las cuatro fuerzas políticas que estamos

lo podamos hacer y sí que me gustaría acabar con las afirmaciones que realizaba la señora

de unos contra otros no estamos hablando de enfrentar a personas y evidentemente la ciudadanía universal está bastante cuestionada pero no precisamente por los grupos que estamos apoyando sino por los grupos como el suyo vulneran los derechos allá donde gobiernan o allá donde expresan sus discursos estamos hablando de derechos humanos sí sí hay unos derechos humanos para todos los seres humanos independientemente

de dónde vivan porque quién es quien alienta a las pequeñas turbas las pequeñas porque la mayoría de la sociedad canaria ha desarrollado

en canarias quién ha alentado a las pequeñas turbas que ha habido en canarias por las redes sociales su partido político

sus amigos de grecia y quién es quien alienta los discursos del odio allá donde gobiernan

orbán o el gobierno de polonia aquí no estamos hablando de seres

de cuatro formaciones políticas y también alguna que va a apoyar parte de los puntos que la diferencia que tenemos es que somos formaciones políticas democráticas

de esa definición pero usted sola las demás estamos aquí
usted es la que sitúa fuera usted defínase a sí misma eskerrik asko eskerrik asko martínez zatón jauna

sí lo que tengo que decir es que seguimos incidiendo en que el flujo migratorio no es un todo homogéneo como aquí quieren dejar patente hay una gran diferencia entre unos migrantes y otros hay diferentes realidades de cada ser humano que llega a nuestro país

primero como he dicho antes ayudemos a los países en origen para mejorar su situación y que de esta forma no se vean abocados a dejar sus países es curioso señor martínez que me hable a mí de derechos humanos claro que los respetamos los respetamos muy bien no como lo que hacen con los que ustedes firman

nunca han defendido los derechos humanos no hay más que hacer un poquito de historia también es verdad que su grupo también alienta todas aquellas manifestaciones violentas contra aquellos que no tienen el pensamiento igual que ustedes

de divagaciones y vamos al centro de la noticia ustedes no alientan la violencia contra el que no piensa igual que usted creo que sí no tengo más que decir gracias

gracias sí gracias presidenta brevemente desde el escaño brevísimamente

sí es normal señor martínez la gestión que esté atribuida a comunidades parte de la gestión

de las cuestiones que tienen que ver con el fenómeno de la migración y del acogimiento de los refugiados

en el ámbito de sus competencias pues qué hacer y qué favorecer todos esos programas pero yo a lo que me refiero es a la gran política al gran marco al gran marco de colaboración y de cooperación entre estados entre ciudadanos entre que se sepa que se conozca que además porque es la referencia clara para lo bueno y para combatir lo malo o sea que yo creo que ese es el elemento fundamental que lógicamente lo que pase en álava bizkaia y gipuzkoa no es diferente de lo que pase en cantabria ni de lo que pase en languedoc segurísimamente ni lo que pase

provincias de europa de españa o sea en ese sentido yo creo que de lo que yo hablo y que a veces soy un poco obsesivo es de que la coordinación y la cooperación

y que luego la gestión claro que sí pero en ese ámbito de marco europeo de actuación ese es el elemento fundamental no y además y ya como otra cuestión porque todos citamos a alguien esta mañana pues yo ayer vi un reportaje a la noche en

de la inmigración precisamente de lo que ocurre en el mediterráneo de lo que ocurre en nuestras fronteras y desde luego

porque me he referido solamente a que hemos llegado a un acuerdo pero no

pues obviamente no les he agradecido su disposición la disposición proactividad para que podamos llegar a este acuerdo así que nobleza obliga

decirle al señor barrio que usted dice que bueno lo que ocurra en distintos lugares como puede ser aquí en burgos en es lo mismo pero sí estoy de acuerdo que puede ser lo mismo pero considero que la predisposición de la sociedad de cada lugar

considero que no es lo mismo tenemos por ejemplo por poner un ejemplo el caso de la cooperación por parte del gobierno vasco

se han convocado subvenciones de treinta y dos millónes

por ejemplo frente a los veinticuatro coma siete millónes de euros en el ámbito estatal con lo cual estoy de acuerdo que puede ocurrir

la predisposición de esos distintos lugares es distinto

consejero señorías bien seré breve porque el interés de este grupo parlamentario en relación con esta cuestión es el que tengamos

interpelación que realizamos a la consejera todos los recursos de salud y sanitarios disponibles para las actuaciones que

en las labores en el análisis en el control de la pandemia en la lucha

para la progresiva desaparición del virus y de sus efectos

todos los cursos disponible para combatir a ese virus y en ese sentido

de nuestra interpelación que ahora se convierte en moción y por eso hicimos ese planteamiento y lo traemos ahora a este pleno

moción en relación con instar al gobierno vasco a que elabore y ahí enmarcábamos la actuación un plan de actuación en el que se organice el sistema y requisitos necesarios para que las farmacias comunitarias

puedan puedan elaborar con el departamento de salud en lo relativo a la realización de test rápidos

dos y también hablamos de la campaña de vacunación a la sociedad con el fin de tener a punto

todos los recursos sanitarios disponibles en caso de nuevas oleadas de contagios

o de programaciones generales de vacunación a la población o de actividades que pueda tener que realizar el sistema

todos sus recursos disponibles nosotros hacíamos esa interpelación esa moción consecuencia de la interpelación y tengo que decir que

las enmiendas que se han hecho a la misma las enmiendas que ha hecho elkarrekin podemos las enmiendas que ha hecho eh bildu y las enmiendas que ha hecho el partido nacionalista vasco

son perfectamente complementarias acordes con lo que yo he hecho en ese planteamiento de poder utilizar y de poder tener a disposición todos los recursos necesarios la enmienda del señor

de elkarrekin podemos hablaba de diseñar y planificar la futura campaña de vacunación frente al covid diecinueve reforzando osakidetza

con los recursos materiales humanos necesarios para garantizar que se lleve a cabo la vacunación desde el sistema público de salud evitando añadir sobrecargas de trabajo al personal vale yo estoy de acuerdo con eso pero lo que yo digo es perfectamente complementario con lo que usted dice perfectamente complementario porque ya se ha hecho

en otras cuestiones o sea que perfectamente complementario y estoy completamente de acuerdo

además garantizar que la venta en farmacias de test de antígenos no suponga disfuncionalidades con la estrategia pública de vigilancia detección notificación y manejo de casos de infección por

completamente de acuerdo porque nunca puede haber disfunciones es al revés

es que haya ayudas que haya cooperación y colaboración y que todo eso beneficie

con lo que usted ha dicho de la misma manera estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho la señora

en su enmienda de totalidad por supuesto

primer punto mostrar el agradecimiento a los farmacéuticos farmacéuticas y a las farmacias en la comunidad autónoma del país vasco por la función que han desempeñado en la vigilancia de la salud de los ciudadanos durante la pandemia completamente

inobjetable es así es lo que ha pasado gracias a que hemos tenido también

importante estructura de oficina de farmacia y de profesionales bien preparados hemos también estado en mejores condiciones para combatir los efectos de la pandemia no cabe ninguna duda o sea ese agradecimiento que luego se ha trasladado a la enmienda de transacción desde luego es suyo y es de agradecer

insta al departamento de salud a consensuar con los colegios

completamente de acuerdo o sea forma parte complementaria de lo que yo he tratado de decir también en relación con lo que pueda haber qué hacer y con

en este caso el departamento de salud entienda que puede hacer en colaboración

y estoy completamente de acuerdo con lo que decía también la enmienda

de los grupos que apoyan al gobierno en el caso de resultar necesaria la ayuda de recursos sanitarios ajenos al sistema público de salud para abordar los test de detección de covid diecinueve en el caso de resultar necesaria

bueno pues se analice esa factibilidad de los mismos tras examinar informes

previsto de que puedan de que se pueda pensar en que las farmacias comunitarias nos puedan echar una mano no es

eso pasa en otras partes del mundo en otros países en relación con esa capacidad en este momento con algunas cuestiones que tienen que ver con los test

planes y programas que pueden ir en ese sentido yo lo que quiero decir claro que no se trata de imponer nada ni mucho menos se trata de abrir marcos de colaboración

con este tema estábamos hablando de dos elementos claves el control de la infección los test

campaña de vacunaciones si es caso por las necesidades de esa misma campaña sí y sabiendo que hay unos profesionales perfectamente preparados para ello

ese era el planteamiento es decir hemos visto también y lo recordaba en la interpelación hemos visto

lugares muy cerca de aquí cómo se hacen esos test cómo se desarrollan

vemos también que lo que nosotros solicitamos como posibilidad y como cauce de colaboración pues

en relación con la operatividad con la capacidad con la formación desde luego que sí con todas esas cuestiones

por su propia capacidad y porque ellos a través de sus colegios lo dicen están

están dispuestas para seguir asumiendo responsabilidades funciones de salud hacerlo además en colaboración

la enmienda de transacción con las comunidades autónomas o con los gobiernos y con los departamentos

ha quedado muy bien y claro y yo creo que ese es el propósito desde luego de seguir avanzando ese

en la aplicación de todos los recursos o por lo menos en la posibilidad de que puedan estar disponibles ese es el elemento fundamental nosotros hacíamos referencia también en la interpelación

científica de farmacia familiar y comunitaria

en relación con responder a una pregunta no por qué realizar test rápidos de detección del coronavirus sars cov también en las farmacias comunitarias no y a esa y a esa

diez puntos o diez respuestas en relación porque en la actualidad es necesario detener la propagación de la covid hemeretzi y hablaba de que ellos estaban dispuestos y eran elemento fundamental o por su además por su capacitación

porque el sistema nacional de salud está bajo una gran presión asistencial bueno hay momentos de gran presión otros de menos presión

participar también y pueden estar dispuestos a hacerlo y también el sistema sabe que puede contar con ellos decía también porque

sanitario universitario capacitado para realizar esos test por supuesto que lo está y además

implementando actuaciones formativas en relación con la

lo están haciendo o sea que en ese sentido no solamente a la formación universitaria y profesional sino que se está implementando

también decía por qué realizar porque son establecimientos sanitarios que ya forman parte del sistema nacional de salud

un elemento más objetivo porque hay una demanda ciudadana creciente las farmacias se pregunta porque se interesan los ciudadanos también porque forma

accesibilidad y cobertura del noventa y nueve coma nueve por ciento de la población es decir es un

con estas cuestiones porque la población confía en el farmacéutico comunitario y eso es verdad y todos lo sabemos porque muchas farmacias ya prestan servicios similares

y de otras que tienen que ver con otras patologías en relación con lo que controlan las farmacias porque un gran número de farmacéuticos comunitarios y farmacias lo están demandando

y porque están en red con el sistema nacional de salud y con el sistema vasco de salud y pueden garantizar la trazabilidad de los resultados de los test y como decíamos el otro día también

hay una serie de cuestiones que yo creo que son

que el sistema puede estar preparado no por eso mismo y después de la presentación de la iniciativa visto

la enmienda de transacción que han presentado los grupos

eh bildu el pnv y partido socialista lógicamente

porque yo creo que dice y recoge lo que yo planteaba en relación

como decía antes y recordaba la parte de la enmienda de eh bildu

es justicia así que está muy bien recogido y se agradece esa aportación

de recursos sanitarios ajenos al sistema público de salud para abordar

el modelo organizativo necesario para lograr una cooperación eficiente en la lucha contra la covid hemeretzi

del tema de la posible implicación en las vacunas pero vendrá del suyo también vendrá del suyo de la misma manera que pasa eso también pueden estar preparados para lo otro o sea que también podría decir a que consensue con los farmacéuticos interesados en colaborar

no solamente en los test sino en las vacunas están preparados pero yo entiendo que esta iniciativa

en un texto interesante a mí me gusta me parece que reconoce a los farmacéuticos y además que se ve la disposición para seguir acordando con ellos posibles actuaciones

estar en el punto de análisis en el tema de las vacunas para su planteamiento pero es posible que

y bueno y votaré a favor de la enmienda de transacción muchas gracias eskerrik asko

señor barrio la verdad es que nosotros en cambio siento diferir de lo que usted ha expresado al inicio de su intervención pero nosotros no consideramos que su iniciativa y lo que nosotros hemos presentado sean compatibles porque nosotros

no compartimos su iniciativa intentaré además

que usted haya expuesto que lo que traen hoy a la cámara es compatible con las enmiendas que hemos hecho todos los grupos

un acuerdo con ninguno desde luego con nuestro grupo no hubiera podido

con lo que están proponiendo nosotros no compartimos su iniciativa en ninguna de las dos cuestiones que plantea en relación a los test y mucho menos en relación a la vacunación en farmacias las farmacias al igual que los profesionales que trabajan en ellas pues sí desde luego cumplen un valioso papel que todos reconocemos

no deben realizarse fuera del sistema sanitario del sistema público

y desde luego la aplicación de las vacunas mucho menos nuestra posición es totalmente frontal a lo que ustedes están planteando respecto a la realización de los test antígenos nosotros pensamos que

pensamos que su iniciativa o iniciativas de ese estilo pues abren la puerta a la posibilidad de que los test antígenos para el seguimiento

farmacias y mercantilicen lo que es la lucha

contra una pandemia que tenemos encima nosotros pensamos que no sería buena noticia renunciar al servicio público para favorecer intereses privados que es lo que podría suponer la propuesta que ustedes plantean seguramente

con ese tipo de planteamientos las farmacias comunitarias efectivamente tienen una función pública pero no hay que olvidar

de negocios privados favorecer la demanda asistencial desbordada sí

para empujar a la población a realizar esa demanda en el sistema privado que es lo que nosotros pensamos que pasaría

que no la consejera que está presente ha afirmado en alguna ocasión

para la vacunación y por lo tanto además nos parece que traer esta iniciativa

en la estrategia pública de vigilancia detección notificación y manejo de casos de infección

de este virus que lleva a cabo osakidetza el sistema público

solo puede traer complicaciones y disfuncionalidades nosotros sí pensamos que lo ustedes proponen traerían disfuncionalidades

porque no es un entorno clínico el usuario

en el sentido mercantil se convertiría en este caso en cliente puede negarse además

se transmita a epidemiología y estamos hablando del control de una pandemia ante la pandemia con tantas muertes

nos parece que no se debe andar con bromas fomentar la medicina privada y no atender a la sanidad pública no vamos a comentar el riesgo de contagio sin entornos sucios y limpios en farmacias de difícil aplicación gestión de residuos

etcétera nuestro grupo y así lo hemos defendido también en otros parlamentos ni siquiera ve cuál es el beneficio de la venta de los test

pero seguramente ese es otro debate pero lo que proponen hoy pensamos que no facilitaría

al contrario pensamos que generaría más carga para la atención primaria y generaría disfuncionalidades

en la sanidad pública de momento que sepamos ese tipo de test en farmacia son de pago como sé que

ya que bajo su punto de vista no son lugares adecuados para ello debido

el lugar donde se toma la muestra ha de ser el adecuado una persona con síntomas no puede estar en el mismo sitio que una persona que por ejemplo va a comprar leche para su bebé los test de antígenos dan positivo en los primeros días cuando la persona tiene una alta cantidad del virus y es más contagiosa con lo que la muestra debe tomarse en un lugar en el que no comparta espacio con personas sanas

la realización e interpretación de estas pruebas además debe hacerse con los profesionales adecuados ni siquiera el personal de enfermería

que reclama que son los técnicos y técnicas de laboratorio los profesionales mejor preparados para procesar visualizar validar y registrar en los laboratorios de microbiología los test rápidos de antígenos por lo tanto ustedes

y farmacéuticos nosotros no estamos de acuerdo y además como le digo

y son consideradas de interés público pero no dejan de ser negocios privados y con la participación

en la vacunación pues nuestra opinión es más de lo mismo o diría peor nos oponemos de manera aún más frontal si se puede a que la vacunación respecto a este virus además nuevo

en las farmacias no son los lugares adecuados para la vacunación señor barrio lo que sí es importante es garantizar

cuente con todos los recursos propios para realizar la vacunación sin tener que recurrir a agentes privados ni actores ajenos al sistema público osakidetza esa es en nuestra opinión la obligación

y del gobierno vasco y eso supone también en nuestra opinión que se debe reforzar osakidetza tal y como dice

enmienda que usted dice que también comparte y es posible no se lo niego efectivamente igual usted podría afirmar no sé qué va a votar sobre nuestra enmienda

no aceptamos no podríamos incluir lo que ustedes proponen que no estamos de acuerdo reforzar osakidetza sí sobre todo seguimos escuchando a las y los trabajadores que están saturados entonces también nos preocupa que vayamos a afrontar una campaña de vacunación tan importante con un conflicto laboral en marcha y una nueva convocatoria de huelga en osakidetza para enero

de la campaña de vacunación sobre todo porque una de las cosas que están diciendo es que hay saturación en las y los profesionales pero la resolución a eso en nuestra opinión no debe ser realizar las tareas sacándolas del sistema sino que debe ser si es necesario seguramente o igual el gobierno

nosotros consideramos que sí pero en cualquier caso lo que se debe garantizar es que se haga desde osakidetza eso es lo que planteamos nosotros en nuestra

no es compatible con lo que ustedes proponen señor barrio nosotros vamos a votar en contra de su iniciativa yo me alegro de que en cambio la nuestra sí les parezca adecuada

nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo de utilizar las farmacias para los test antígenos y desde luego no estamos en absoluto de acuerdo

las farmacias en los procesos de vacunación eskerrik asko hernández jauna

yo creo que en primer lugar debemos aclarar algunas cuestiones para centrar fundamentalmente

en duda ni mucho menos ni la buena voluntad ni la predisposición de los farmacéuticos para desarrollar su buena labor y su buen quehacer también en el ámbito de la lucha contra el covid ese no es el debate porque todos estamos de acuerdo

crucial de la promoción de la salud y porque todos creemos que la

seguir siendo muy muy estrecha y que eso es imprescindibles si queremos desarrollar el mejor servicio a la ciudadanía pero formas de colaboración hay muchas

en la iniciativa que nos ha traído el partido popular lo que se plantea es la posibilidad de que estas oficinas de farmacia desarrollen un papel activo en lo que sería

campaña de vacunación y aquí en esto sí que existe un debate en lo anterior pero en esto sí existe un debate que es un debate que está abierto y que hoy en esta cámara pues también vamos a desarrollar pero yo creo y por eso decía que lo iba a intentar concretar los ámbitos del debate

el debate en sí mismo está en relación a la propia utilización de los test de antígenos no ya

a si tienen o no tienen que entrar si deben si sería bueno las farmacias u operadores ajenos al sistema público sino en qué situaciones son

porque creo que igual no quedó claro en la interpelación por parte

hay una idea que tenemos que desechar la unión europea en ningún caso está promoviendo el uso masivo de los test de antígenos en ningún caso eso no es así porque bien la traslación en medios de comunicación que se podía

recomendaciones del consejo europeo yo las he traído aquí y a mí me gusta mucho ir a las fuentes para entender perfectamente

doce nos dice que los estados miembros están planteando cada vez más

principalmente en entornos médicos primera puntualización en el punto trece

útiles para el diagnóstico de la infección por covid

aún no es óptimo y se debe actuar con precaución punto catorce entre los modelos existentes habla de los requisitos mínimos de sensibilidad que la señora

dijo en la interpelación dice que son útiles cuando las pruebas de pcr sean temporalmente limitadas la capacidad de acceso a las

impida su utilidad clínica luego esto se desarrolla en la siguiente

en esta recomendación de dieciocho de noviembre la comisión europea reitera cada uno de los puntos anteriores

asintomáticas punto trece de la resolución y nos ofrece un punto entero que yo creo que es lo más destacable relativo a los entornos

de las pruebas de antígenos y nos dice primero

segundo cuando se realice en entornos con una proporción de positividad de igual o superior al diez por ciento

en el momento de admisión en centros sanitarios o cuando se aplique un enfoque centrado en la realización de pruebas a toda una población determinada por ejemplo en una comunidad local

y yo creo que esto es muy importante y en el contexto de medidas restrictivas con el objeto de detectar a las personas con un elevado potencial de transmisión comunitaria

ambas recomendaciones dicen muchas más cosas que nos fueron explicadas por la consejera sagardui y en las que no voy a incidir pero yo creo que lo dicho

de que al menos por el momento los test de antígenos son recomendables

bien determinadas por ejemplo para las situaciones que se vienen usando ya en euskadi y que en ningún caso vuelvo a repetir la ue esté aconsejando el uso masivo con carácter general de test de antígenos para hacer frente a la expansión

dicho ya esto y teniendo por tanto clara esa importante prevención podemos entrar a valorar la posibilidad que propone el grupo popular respecto a su posible realización en farmacias pero para analizar esta posibilidad debemos partir del escenario que acabo de plantear conforme a las propias resoluciones del consejo de europa que no dejan de ser por cierto

y en este escenario en primer lugar si bien es cierto que la realización de pruebas de antígeno en las oficinas de farmacia permitiría aumentar las capacidades diagnósticas hay que tener en cuenta

que se deben seguir estrictamente las instrucciones de uso del fabricante y realizarse durante los cinco días posteriores al inicio de los síntomas o siete días después

si bien la red de oficinas de farmacia puede ser un recurso comunitario en las actividades de detección precoz en la infección activa por covid es necesario subrayar que la recomendación europea antes mencionada

deben realizarse por personal sanitario y de laboratorio capacitado para llevar a cabo la toma de muestras el ensayo la interpretación de los resultados

solo de este modo se puede garantizar que la toma de muestras es correcta los productos son adecuados la realización de la prueba no conlleva riesgos para el profesional pacientes o terceros y que se produzca una correcta interpretación de los resultados y de las medidas a adoptar en este sentido debe asegurarse que la distribución del producto es para uso por profesionales sanitarios

de análisis clínicos así mismo en el caso de estos productos está prohibida su venta al público y a través de medios telemáticos resumiendo el debate no es tanto si las farmacias deben o no deben tener un papel activo en la realización del test de antígenos el debate real

el escenario actual aconseja tener un criterio de prudencia y mucho más referido a si se deben o no incorporar agentes externos

sistema sanitario público las propias recomendaciones de la comisión europea desaconsejan al menos por el momento

o para momentos de administración en centros sanitarios o en escenarios de positividad superiores al diez por ciento tal y como se viene usando por ejemplo aquí en euskadi con el escenario dibujado

a nuestro juicio es no tener una posición cerrada seguir analizando y validando las distintas pruebas diagnósticas que aparecen en el mercado garantizando un enfoque común europeo y actualizando la estrategia de detección precoz vigilancia y control del covid diecinueve siempre

y de manera consensuada en el consejo interterritorial del sistema nacional de salud

la realización de pruebas de detección de covid diecinueve directamente por los recursos propios del sistema sanitario y esa es nuestra preferencia que quiero que quede clara

que le digo si fuera necesario contar con la ayuda de recursos sanitarios ajenos al sistema público de salud no me cierro

la factibilidad de analizar el papel a desarrollar por las farmacias siempre conforme a la evidencia científica

y por supuesto con consenso dentro del consejo interterritorial del sistema nacional de salud y en relación a la vacunación para finalizar tal y como

no contemplamos que la vacunación se haga fuera

sobre todo por cuestiones objetivas estamos preparados para hacer frente desde nuestro sistema público a la vacunación

que por lo que ya sabemos va a ser escalonada no va a ser una vacunación no va a ser una vacunación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

eguerdi on guztioi vaya por delante señor barrio que me alegro por el apoyo que nos ha anunciado a nuestra transacción aunque eso

que le recuerde que si bien la persistencia es una virtud llevada a la hipérbole

y eso a veces ocurre porque a nada que alguien vuelva a escuchar la interpelación hecha a la consejera de salud la que dio fruto a esta moción cualquier lector le queda clarísimo cuál es la posición del gobierno al respecto y por tanto salvo que lo único que se pretenda es persistir para volver a mostrar lo que ya enseñó pues no se entiende

casi textualmente así evito repetirla con una dialéctica inventada hombre ya sé que no es las poesías y la literatura ni celaya que hemos escuchado esta mañana aquí porque esto es bastante más

pero lo voy a hacer ante su afirmación en la interpelación de que y cito textual el señor illa abrió la puerta

esa puerta se abrió pidiendo a las comunidades autónomas que quieran implementar esta medida

la consejera de salud le contesto y vuelvo a citar la textualidad yo matizaría mucho esa afirmación porque se trata de una manifestación realizada por el ministro de sanidad en la de la comisión territorial del dieciocho de noviembre a la que yo asistí y lo que allí dijo el ministro en primer lugar

y a renglón seguido explicó que de la misma manera tampoco compartía la realización de esos test de antígenos en farmacias pero que si alguna comunidad

un informe muy detallado sobre cómo pensaban realizar un informe muy detallado de protocolos un informe muy detallado de la gestión de pruebas un informe muy detallado de la información generada que el ministerio estudiaría eso fue lo que dijo el ministro en la conferencia sectorial

finalizó esta parte de su intervención diciendo por tanto actualmente las tramitadas en euskadi no cumplen los requerimientos legales vigentes y terminó su intervención diciendo de forma resumida

la colaboración con ellas es muy estrecha e imprescindible y nuestra voluntad es seguir mejorando esa relación

activa de las farmacias cualquiera que hubiera asistido a aquella interpelación en directo ya habría sacado la clara conclusión que de momento la ue el ministerio español del ramo

con los mejores ojos extender la realización de pruebas de detección de covid a las farmacias sin con ello

que las farmacias cumplen en el sistema global de salud no obstante y continúa con aquella interpelación en su segunda intervención usted señor barrio

bueno gracias por sus palabras y veo que hay una puerta abierta no sé si antropológico o no pero usted es un optimista de es un optimista

la señora consejera en su segunda intervención comenzó diciendo señor barrio de verdad que me sigue usted sorprendiendo claro

le habló de las vacunas de la posibilidad de que también las vacunas pudieran realizarse en farmacias

y tras una larga intervención sobre la materia terminó diciendo así

un cincuenta por ciento más que el año anterior y la campaña aún no ha terminado tenemos la logística el personal y la experiencia de manera que no creo que sea necesario recurrir a las farmacias para administrar la vacuna de la covid hemeretzi y escuchado esto

nos presenta la moción en la que pide al gobierno vasco que organice ya un plan con los requisitos necesarios para que las farmacias puedan realizar test rápidos de antígenos de covid y proceder a vacunaciones cuando sea necesario

no sé podía haber escuchado a la consejera escuchar lo que dice el ministerio lo que dicen las autoridades comunitarias etcétera

y votarle con coherencia que no a lo que usted proponía pero hemos preferido presentar una enmienda en la que volvemos a dejarle negro sobre blanco lo que pensamos sobre el tema lo que piensa el gobierno vasco también

solo en el caso de que el sistema sanitario público se vea en la necesidad de apelar a otros subsistemas sanitarios para la realización de pruebas lo puede hacer pero siempre considerando todas las recomendaciones del centro europeo de la oms de

y supongo que usted porque lo ha dicho estará de acuerdo conmigo no sé si la suya y la nuestra son complementarias o no pero parece que está de acuerdo con nosotros

a las farmacias por su mejor intención y lo décimos en nuestra transacción usted dice la diferencia es así

y nosotros que no hace falta aunque en caso de que haga falta se hará siguiendo unos requisitos

porque hacerlo cuando lo que prevalece es que no se les va a requerir es trabajar sin sentido y haciendo pensar que van a hacer falta haciéndoles pensar que van a hacer falta

la suya es una moción en la que las farmacias piden colaborar y la nuestra una enmienda en la que décimos que gracias pero que no pensamos que hagan falta porque el sistema público es suficiente

usted hacer las normas y luego si eso a ver si se aplican y nosotros esperar a ver si hacen falta y luego en función de que haga falta y qué

pero sabiendo todos que cuando haga falta habrá que superar unos criterios generales que son los que aparecen en nuestra enmienda y otros específicos que hoy desconocemos porque no sabemos exactamente cuando llegue ese momento de requerir a las farmacias qué test va a ser si va a ser con sangre si va a ser de saliva no sabemos y por tanto

hay países que lo hacen países que no comunidades que lo quieren poner otras no otras están esperando yo ni me voy a referir ni a unos ni a otros ni a los mediopensionistas

y un sinfín de diferencias que nos obligan a analizar nuestra realidad y a decidir sobre ello

pues qué ventajas puede aportar que lo hagamos en farmacias no vamos a darle más vueltas al tema y con el objetivo de

hemos propuesto en la enmienda y luego una transacción en la que mantenemos la posibilidad de que las farmacias puedan colaborar usted

porque además como sé que es un optimista pues le voy abriendo el camino para que en su optimismo siga

independientemente de que cada región y país del mundo vaya a hacer lo que le parezca óptimo lo que es lógico

nuestra transacción es lógico no puedo terminar sin explicar que aunque le gusten todas las enmiendas desde mi punto de vista son algo sutilmente diferentes

usted es hágase la norma y luego si eso que se aplique y que las farmacias lo hagan y nosotros esperemos a ver si hacen falta y si hacen falta haremos una norma

un sector privado en esta operación y forma parte de la ideología y me parece razonable por eso son

si no en algún caso profundamente diferentes y no voy a terminar mi intervención sin agradecer de verdad

y vuelvo a insistir lo que dije el jueves pasado de que espero que este sea un camino que continúe que no sea solo fruto digamos del espíritu prenavideño que poco a poco aunque no tengamos ni bolas ni árboles por aquí pues nos vaya

gracias presidenta muchas gracias pues sí la verdad que puedo ser un pesado optimista no sé usted señor tellería ha estado triste pero con gracia la verdad que con gracias porque

no normal es decir ser pesado hacer una interpelación y luego hacer una moción

se puede ser pesado pero estás convencido de lo que haces o crees que estás

contribuyendo en un caso como este a facilitar recursos a facilitar posibilidades de actuación en dos ámbitos que nosotros contemplábamos además lo hacíamos como teóricamente sobre los test y la aplicación y la práctica de los mismos

lo hacíamos como en un marco de prevención de análisis de posibilidad de actuación y por eso habíamos sido escrupulosos en la iniciativa y en la moción por eso hablábamos de que instábamos al gobierno vasco a que elabore un plan de actuación en el que se organice

o sea y ya está al gobierno vasco para la colaboración entre esas farmacias y el departamento de salud en lo relativo a la realización de lo que ya hemos hablado con el fin de tener a punto

de nuevas oleadas de contagios o sea estábamos hablando de un planteamiento de una posición de una programación de una posibilidad

o puede ser conflictivo y complicado y entonces nosotros hacíamos ese planteamiento teórico de colaboración efectivamente ya sé que eso igual puede ser un poco previo o que igual no se tiene que dar pero igual sí se tiene que dar y entonces en ese marco de análisis de las cosas que tenemos o no podemos hacer pues es como habíamos planteado nosotros esta iniciativa usted llegó el otro día le escuché perfectamente a la consejera señor tellería hoy no he hablado yo del señor illa o sea yo no he hablado del señor illa en la prensa lo que el señor illa había dicho y la consejera me dijo lo que había ocurrido en el consejo interterritorial y escuché a la consejera

veremos qué planes me presentáis y cómo se analizan esos planes y si son buenos si son positivos se aprobarán se debatirán y veremos a ver si eso es factible pero en cualquier caso yo

ese es el vértigo habitual a la colaboración público privada en el ámbito de la sanidad no y bueno y es ese planteamiento el que nos hace no no desde luego que no y que nos vamos a oponer en cualquier caso no

no es un planteamiento positivo de cara a esa utilización posible

la colaboración público privada de una manera esencial en relación con muchas cuestiones y lo han hecho además con cosas muy complicadas

de análisis de analíticas en colaboración o sea que en ese sentido yo creo que hay precedentes interesantes

vuelvo a decir que estoy completamente de acuerdo porque lo que usted habla es de reforzar el sistema público si yo también hablo de reforzar el sistema público pero no niego la posibilidad de la colaboración público privada es decir y en eso estoy abierto a lo que pueda pasar a los test

su planteamiento porque ha sido muy ilustrativo y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho no además es que formas de colaboración hay muchas usted lo ha dicho yo

que se pueda organizar no que se tenga que realizar pero que podamos estar preparados para un colectivo que está dispuesto pueda ser utilizado en una serie de requerimientos sociales de primera necesidad como eran estos o sea ese es el asunto

totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho de que si hay que hacer si hay que dar un paso todas las garantías

todos los medios de control por eso hablo yo y por eso hablaba de realizar un plan

de decir no no que las farmacias hagan esto desde aquí el parlamento vasco insta a que no no no a que vamos a colaborar y vamos a prever

ese es el elemento fundamental de nuestra iniciativa esa posibilidad vuelvo a decir he sido y también y también llevaba esto la enmienda de transacción quiero decir que me

a este análisis a este debate que yo creo que es muy interesante y a ver que la mayoría entendemos

se tiene que hacer cargo de todo lo que pueda venir pero que hay un elemento colaborativo esencial que son las farmacias

así que es posible que las tengamos que utilizar muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

el señor barrio del partido popular de vamos a hacer en la transacción que han firmado

hablan no sé exactamente los términos que han utilizado

entonces recurriremos a esa colaboración bueno nuestra posición en realidad o la enmienda que hemos presentado

a otra diferente posición es vamos a evitar que tenga que pasar esto vamos a evitar que haya que recurrir a es decir por eso nuestra iniciativa era de reforzar osakidetza no por volver a dar la matraca yo también soy

se lo digo a usted con estos temas pero nosotros incluimos hoy lo de reforzar osakidetza precisamente por esto porque si ese era el debate

si vamos a tener que recurrir o no recurrir a determinados agentes externos al sistema público de salud por mucha colaboración

porque son las que hay por mucho que les reconozcamos esto nosotros pensamos que lo que tenemos es que en todo caso

que recurrir a eso por lo tanto sí puede ser nuestra posición una cuestión ideológica pero no solo una cuestión ideológica

a esto las farmacias no son el ámbito adecuado para la realización de estos test y mucho menos para llevar a cabo la campaña de vacunación

nos oponemos a su iniciativa sí es verdad que yo le reconozco señor barrio

por aquí pesado yo me sumo a eso en el buen sentido de la palabra

uno tiene que traer aquí los planteamientos lógicamente nosotros ustedes y nosotros no vamos a coincidir en ese planteamiento pero yo sí le recojo el guante en una cosa que pues mi grupo trabajará para traer a la cámara seguramente entonces usted no esté de acuerdo por qué no trabajar para tener farmacias

por ejemplo que no existen en el ámbito hospitalario existe pero no existen las farmacias públicas en el ámbito ambulatorio que a nosotros nos parecería un servicio público de primer orden bueno yo le recojo el guante y ese es un debate que me gustaría también

a esta cámara para que vea usted que no le considero un pesado aunque no esté en absoluto de acuerdo con la posición que ha traído el partido popular ciudadanos hoy a esta cámara

gracias señora presidenta bueno yo por solidaridad me autorreivindico pesado también y así quedamos todos en empate a pesados pero fundamentalmente

en el que yo creo que es bueno que ejerzamos una cierta labor pedagógica desde los escaños que ocupamos y yo creo que hoy aquí se ha ejercido

y me parece interesante yo creo que es importante que a la ciudadanía pues eso que he comentado en un principio en primer lugar el debate no es

y el desarrollo que se va dando según va evolucionando las propias pruebas de las que disponemos los propios laboratorios que van poniendo en marcha nuevas pruebas

de acierto pero que en el momento pues no es así por eso la unión europea lo que hace es decir aquí establezco unas recomendaciones por cierto recomendaciones que hace porque empieza a ver que hay países que las empiezan a utilizar

si las están utilizando diferentes países de la unión pónganse de acuerdo en cuáles son los criterios de uso

se haga ese tipo de pruebas pero la parte sustancial es que la propia unión europea en estos momentos avisa este no es el camino para el despliegue masivo de las pruebas de detección del covid es decir

y hay algunos momentos concretos en los que sí puede estar indicado este uso de

de antígenos yo creo que ese es el camino por el que tenemos que seguir avanzando lo expresaba muy bien el señor

nosotros creemos que no tiene que llegar a suceder ese momento en el que se tenga que ir a un agente externo al propio servicio público en este caso de osakidetza pero bueno esto es en relación a cualquier servicio público de españa

para la propia campaña de vacunación esa es la gran diferencia

efectivamente el convenio de colaboración que fuera necesario o ver con las personas implicadas cómo se podría pero solamente en ese caso el objetivo tiene que ser que no sea necesario

y para terminar yo quiero también aprovechar ya que

en relación a las diferentes pruebas de autodiagnóstico y algunas noticias que se están

este ámbito en estos momentos en la reunión del consejo interterritorial de ayer se adoptó por unanimidad y a mí me parece muy importante destacar cuando se adopta por unanimidad

que es el de recomendar a los profesionales de la salud que no recomienden el uso de estas pruebas autodiagnósticas a la ciudadanía

eso es lo primero que tenemos que tener claro por lo tanto yo creo que aquí hay un elemento básico de consenso que es que todos estamos a que desde lo público se haga frente

y luego hay un consenso no compartido por todos los grupos de que solamente en el caso de que fuera necesario acudir a sistemas

externos al sistema público pues sería necesaria una organización que en cualquier caso

si llegáramos a una votación ganarían los admiradores de los pesados está bien pero que en ningún momento he llamado pesado a

la persistencia es una virtud llevada a la hipérbole es pesadez y eso es vicio

y simplemente he mostrado mi sorpresa porque con una interpelación en la que se le interpela a la sailburu exactamente sobre algo y la sailburu contesta exactamente sobre eso volvemos a encontrárnoslo como moción se puede hacer pero es insistir es persistir a la siguiente le llamaré pesado todavía le he hablado de persistencia de virtud la siguiente es vicio y que sepa señor hernández que no me gusta la pesadez a mí no me gusta pero eso en cada uno es subjetivo porque hemos llegado a un acuerdo

la diferencia entre su propuesta y nuestra enmienda transaccional no es solo sutil es gruesa es gruesa usted dice hágase un plan para que las farmacias puedan entrar y luego cuando sean necesarias que se utilicen y nosotros décimos no no son necesarias creemos

si son necesarias esa es la diferencia le parecerá sutil pero no pero es que además no enfrentamos

requerir farmacias vaya usted a saber por qué podemos necesitar farmacias

era mucho menor el volumen de enfermos era de otro grado era totalmente distinta la analítica pero con el sida se utilizaron las farmacias y saben quiénes propusieron

ustedes ustedes lo hicieron lo propusieron y lo

había unas razones de ser hacía falta un cierto anonimato que en los centros de salud no estaba tan garantizado

sin que estuviera osakidetza colapsado por eso nosotros no hablamos de enfrentar el colapso con la necesidad de las farmacias sino buscar

qué va a ocurrir porque aquí no sabemos lo que pasa de un día al siguiente ni qué nuevos diagnósticos hay ni qué circunstancias ocurren

si las farmacias siempre han sido colaboradores de la administración sanitaria pública siempre lo han sido

eso es lo que hemos intentado plasmar en nuestra enmienda sin que en ningún momento estemos pensando que no haya que previamente y prioritariamente reforzar la salud pública

y pidiéndoles que sean prudentes que no viajen mucho

pisua duelako la industria vasca del automóvil genera una

empleos cuarenta mil de ellos en la comunidad autónoma vasca lo que supone

del empleo total si vamos a los sectores exportadores de este país y hay que recordar que nuestro superávit comercial es una de las bases de que podamos aquí tener

de servicios sociales en el entorno al menos del estado español

capítulos de exportación nos encontramos con que por orden el primero es

y accesorios de vehículos automóviles tercero vehículos automóviles para el transporte de mercancías cuarto aceite refinado de petróleo y quinto neumáticos nuevos de caucho es decir la base de nuestras aportaciones son productos ligados a la automoción y muchos otros que no aparecen aquí

también tienen una importante ligazón con el sector de la automoción los cinco mil millónes de superávit que tenemos en la balanza comercial anualmente o por lo menos en el último año están basados en buena medida

del sector de la automoción y cabe decir además y esto es una razón más para acelerar la transición energética también en el ámbito de la exportación que esos cinco mil millónes de superávit serían ocho mil si no tuviéramos

asociados a la importación de productos fósiles en buena medida para el sector de la automoción por tanto creo que con estos datos queda evidenciado una vez más algo que creo que en esta

automoción es una pieza fundamental de nuestro tejido industrial y por tanto de nuestro tejido económico

sobre la electricidad la electricidad y la electrificación del automóvil no es el futuro es un presente que ya ha comenzado y que va a crecer y está creciendo de forma exponencial valga para ello un dato las ventas en septiembre en alemania de vehículos automóviles

nos encontramos con que todavía efectivamente gasolina y diesel tienen la mayoría de las ventas

ya tienen un ocho por ciento de cuota de mercado y los

tienen un siete coma seis los híbridos normales tradicionales un doce coma ocho por tanto casi un treinta por ciento ya son

eléctricos en alemania en el año septiembre de dos mil veinte es decir está pasando sobre la aportación de los vehículos eléctricos a la contribución a la lucha contra el cambio climático también hay un debate porque de forma recurrente se habla que los eléctricos también contaminan y efectivamente los eléctricos también contaminan

que se utilice para producir la electricidad que les alimenta

tal y como nos referiremos a continuación la nueva movilidad no pasa por la sustitución de vehículos térmicos por vehículos eléctricos eso es solo una parte de un proceso mucho más amplio pero contaminan muchísimo menos que lo que contaminan los vehículos térmicos en esta línea que probablemente no verán

las dos primeras columnas suponen la emisión de vehículos diesel y gasolina incluyendo las

a partir de aquí son las emisiones totales de la vida y del consumo de un vehículo eléctrico en función del tipo de producción que tengan sus baterías el vehículo

energético como el polaco o el alemán que está muy basado en el carbón en el peor de los casos el polaco las emisiones totales son un treinta por ciento menor un cincuenta y seis por ciento menos

y un sesenta y tres por ciento menos es decir la tercera parte de emisiones

llegando a un ochenta en el caso de suecia y además con la ventaja de que efectivamente como la producción de electricidad tiene mucho peso y esperemos y así están hechos todos los planes y proyectos europeos va a ir ganando peso en la producción mediante sistemas limpios y renovables por tanto eso irá todavía mejorando elektrikoa izango da

las inversiones que prevé en los próximos años para la electrificación y modernización de su estrategia y de su gama

millónes de euros prácticamente todo el pib de esta comunidad invertido en desarrollos tecnológicos y en desarrollos de nuevos productos treinta y cinco mil millónes para el diseño y fabricación de coches eléctricos

para sistemas de hibridación que pueden ser complementarios durante la transición hasta una plena electrificación del parque automovilístico

de hecho con el idtres que es el primer vehículo de masa eléctrico que han lanzado

con el software del vehículo y eso les ha retrasado durante varios meses la puesta en el mercado por tanto nos están dando pistas treinta y cinco mil para electricidad once mil para hibridación

setenta modelos eléctricos puramente eléctricos previstos de aquí a dos mil treinta

la movilidad del futuro va a ser con ese coche eléctrico autónomo compartido conectado y periódicamente actualizado

den prioridad al peso de lo público en la movilidad si alguien cree que la movilidad del futuro es sustituir los coches térmicos por coches eléctricos está equivocado

a lo largo de esta década quizás algunos años más van a ir transicionando hacia la electrificación pura

hidrógeno pero no solo se trata por el volumen de materiales que se requieren por el grado de ocupación del espacio público que supone la privatización del transporte la movilidad del futuro implica también

movilidad pública y compartida el hidrógeno tiene su papel y tendrá su papel ahora parece que es el concepto de moda aunque creemos que hay que tener cuidado cuidado porque no todo el hidrógeno es de color verde y cuidado porque el hidrógeno no es un eficiente vector tiene muchísimas pérdidas de energía

hasta su uso y a día de hoy el sistema eléctrico de baterías que está a punto de empezar un salto exponencial en cuanto a superar todos los problemas que tiene de precio de peso

y aun así está mucho más desarrollado a la espera de la aparición de las baterías de estado sólido que van a estar ya el salto definitivo

y creemos que el hidrógeno a día de hoy y con el nivel de desarrollo tecnológico que tiene

vehículos aviación marinos naval etcétera y no para el transporte particular

de la escisión en las cadenas de valor entre los países donde están los oem los fabricantes de vehículos finales y los que son más

ensambladores de vehículos de empresas extranjeras y eso puede ser muy peligroso tenemos una serie de retos que es necesario organizar y dar respuesta como país necesitamos buscar enumeraré brevemente los más importantes aunque hay muchos más y por eso precisamente la petición de crear una ponencia específica para el estudio de la cuestión

debemos buscar la continuidad el asentamiento de los productores

fabriquen e instalen aquí en nuestro territorio coches eléctricos fábricas de coches eléctricos y de componentes para coches eléctricos debemos reordenar el tejido productivo para orientarlo al futuro

en el mundo del automóvil fortalecer la convergencia del sistema educativo con las nuevas necesidades

desarrollar un mercado interno también para los coches eléctricos que está en mantillas por la falta de impulso político desarrollar otras formas de movilidad pública alternativas y sostenibles apostar por la instalación de gigafactoría en este país que sabemos que es el dorado que están buscando todos los gobiernos pero que hay que convertirlo en un reto

multiplicar el diálogo con los agentes públicos y privados empresariales y sindicales para alinear fuerzas en torno a una hoja de ruta compartida que nos permita mantener el liderazgo industrial y el empleo en este sector trascendental e implementar modelos de fabricación inteligentes para adaptarnos a las necesidades del futuro

negar que el cambio se está dando se puede decidir se puede y se debe decidir ser partícipe y ser líder de ese cambio no se puede retrasar lo inevitable ni tapar un dedo

que apresurarnos para liderar el futuro y eso requiere también de una aportación desde las políticas públicas

y este parlamento podría y debería hacer como hizo en la pasada legislatura poner en marcha una ponencia para un debate sosegado y hacer unas recomendaciones útiles en esta dirección

gracias señora presidenta señorías bueno estamos de acuerdo en bastantes cosas en este tema del sector de la automoción

y ya anuncio que discrepamos en el tratamiento estamos de acuerdo de entrada

muy importante tiene un peso muy importante en la economía vasca y esto ha sido una gran ventaja en el pasado

puede convertirse en una oportunidad pero el análisis de qué está pasando exactamente en el sector de automoción también lo compartimos no

un cambio estructural un cambio disruptivo que tiene muchas características pero yo señalaría básicamente tres primero es un cambio global el mercado de automoción no es un mercado local

y este cambio se está produciendo en todo el mundo en todo el mundo quiere decir en todos los continentes del mundo no es un problema por tanto exclusivo ni focalizado en euskadi aunque a veces algunas personas piensen y actúen como si fuesemos el centro de universo y el hecho de que sea global limita

lo que sí que podemos hacer siempre es plantearnos que actitud adoptamos ante él básicamente si nos resistimos o nos adaptamos pero es un cambio global

segundo es un cambio pendiente es un cambio de alguna forma retrasado

podemos ver con facilidad que este es uno de los sectores que menos ha cambiado en las últimas décadas a pesar de las aparentes mejoras de los coches

pero no ha habido cambios aquí de paradigmas sustanciales

recuerden cómo iban a ser los coches de futuro efectivamente iban a ser voladores

pues era dos mil diecinueve hace ya dos años

es evidente que ha habido importantes fuerzas de resistencia quiero decir voluntarias que han retrasado el cambio

ni ese es el objetivo pero finalmente no se pueden poner puertas al campo y el cambio parece que va a terminar por imponerse con fuerza estos cambios globales

pero cuando arrancan son imparables porque tienen una enorme inercia la tercera característica del cambio que se está produciendo en el sector de la automoción es que es un cambio que genera importantes oportunidades porque de alguna forma

pero digamos que ahora es el momento o todavía estamos a tiempo de posicionarnos fuertemente en este asunto pero

ya que no es posible por ejemplo vislumbrar con claridad cuál es el escenario final en el que se va a situar el mercado cuál va a ser

de transporte individual o colectivo que vamos a tener y es que seguramente no va a haber un necesario final seguramente

muy atentos a los cambios continuos de las tendencias que irán transformándose seguramente

para que vayamos adaptando rumbo a los cambios que van a irse produciendo

por tanto esta no es una historia de una catástrofe puede serlo si no hacemos nada o si no hacemos lo adecuado

de una gran oportunidad y tampoco es consecuencia del covid

aunque es verdad que el covid pueda acelerar algunos cambios el covid y la crisis económica que produce siempre hace que las empresas más en crisis

como ha dicho el señor casanova hay tres tendencias claras

vehículos energéticamente sostenibles a corto plazo efectivamente parece que se impone

está por ver todavía la potencia y el desarrollo de la tecnología del hidrógeno que va por olas

apunta mejor y hay momentos ahora en los que parece que apunta peor pero todavía no sabemos qué papel va a jugar exactamente

han pasado de ser una utopía a una realidad en poco tiempo

es como una enorme ola de agua que está siendo retenida por una presa en cuanto se solventen algunos problemas

en realidad son algo así como ordenadores con ruedas y en ese sentido

tecnología de visión computarizada tienen un inconveniente también grave y es que requieren

de muy grandes inversiones para adaptar la red de carreteras etcétera en realidad el coche autónomo bueno pues va a requerir

donde apuesten más decididamente por la inteligencia artificial la inteligencia artificial va a ser seguramente un tema

en poco tiempo la inteligencia artificial es un tema al que creo que no le estamos dando la atención necesaria y va a venir de la mano del coche autónomo pero no solamente va a afectar al tema del coche autónomo

que se han posicionado de manera muy vanguardista en este tema que llevan importante ventaja y que han incorporado

líneas de estrategia gubernamentales más importantes la tercera tendencia

los vehículos compartidos efectivamente con diferentes modelos porque tampoco está claro cuál va a ser exactamente la forma en la que esto

de hongos en las que aparecen ahí diferentes alternativas pero por dar un solo dato

el concepto de movilidad como servicio más por sus siglas en inglés

con un clic en nuestro teléfono móvil y esta es la tercera tendencia a la que no podemos

ante este escenario que no es un ejercicio de prospectiva sino de análisis de la realidad nos tenemos que plantear las siguientes preguntas es decir hasta aquí parece que estamos de acuerdo en el diagnóstico esto lo ve casi cualquier analista la pregunta es va a ser posible para euskadi

posicionarse en el futuro de manera destacada en el sector de automoción de manera destacada hombre siempre nos pueden caer las migajas eh pero va a ser posible posicionarse de forma destacada

estamos seguros de que una apuesta decidida por el sector de la automoción futuro tal como está el panorama

es la mejor elección estratégica para euskadi por ello consideramos que ante este tema la solución no consiste en hacer otra ponencia parlamentaria que dure otros dos o tres años

no podemos perder dos o tres años en un tiempo crítico para posicionarnos

quizás llegar a la conclusión de que ya vamos tarde y mal y de que no tiene remedio y que mejor que busquemos

ya se lo han comido los que han ido más rápido no nos engañemos este tipo de ponencias son caras

y con frecuencia son completamente ineficaces respecto al objetivo

y se convierten además en un producto al servicio de algunos grupos por otra parte pensamos que no le corresponde al parlamento buscar la mejor estrategia para que euskadi compita en el concierto internacional sino al ejecutivo

que el gobierno lidere repito que el gobierno lidere esta iniciativa y presente en los próximos meses un plan estratégico que permita responder a la pregunta de cómo va a competir euskadi en el concierto internacional dentro de por ejemplo diez años

y aprovechando los expertos las consultoras las universidades y los organismos de los que tenemos

la ilusión de la ciudadanía y de sus fuerzas políticas y sociales que merecen y necesitan un gobierno vasco capaz de liderar la sociedad en este tema y en otros con altura de miras en vez de lo que un gobierno acomodado y envejecido desgastado por cuarenta años de gobierno y sin capacidad para salir de los esquemas de pensamiento y de conducta que los ha traído hasta aquí muchas gracias

nosotros pensamos que todo aquello que compete a un ejecutivo

compete al parlamento en cuanto a control seguimiento impulso

en este asunto la ponencia que propone el señor casanova que como efectivamente ha dicho ya se aprobó en este parlamento en la anterior legislatura y el adelanto electoral pues acabó con la misma ponencia y por lo tanto desde luego nuestro grupo que en aquella ocasión también respaldó esta iniciativa y también llegamos a un acuerdo con eh bildu pues vamos a seguir manteniendo

la misma posición a mí mi madre de pequeño me daba mucho la matraca

la verdad es que la vida me demostró que tenía razón si empiezas una cosa

estaba en marcha no pudo seguir por el adelanto electoral pero desde luego sería bueno que se pusiera ahora en marcha y aunque ahora hay unas mayorías diferentes y los grupos que apoyan al gobierno tienen mayoría suficiente para tumbar en este caso la iniciativa nosotros pensamos que sería una buena decisión que hubieran cambiado de opinión y permitiesen la puesta en marcha

sus trabajos en la anterior legislatura y la utilización que cada grupo pueda

para sí mismo pues es la misma que utilizamos todos los grupos en los diferentes debates que pueda haber en este parlamento no debería haber no debería haber miedo a eso y en esa ponencia

también para poner un poco los argumentos de por qué creemos que es importante esta ponencia

no se ha hablado tanto de los cambios que efectivamente va a sufrir necesariamente el sector y que en eso creo que estamos de acuerdo yo creo que todos los grupos pero al menos los que hemos intervenido

se están fabricando cada año un millón o millón y medio más de vehículos de los que se venden es decir a día de hoy globalmente existe ya una sobre producción en la en los

pues a estar en regímenes de producción del treinta del cuarenta o del cincuenta por ciento de su capacidad real mantener esa

requiere además que los usuarios renueven continuamente el parque móvil que básicamente ha sido pues una de las principales políticas que sobre esta cuestión

diferentes gobiernos todos los gobiernos los planes renove etcétera

la tendencia no se va a reducir sino que según se asiente la famosa industria cuatro punto cero pues se va a implementar

automatización por parte de los trabajos que ahora son más de tipo manual

es decir realizar en un mismo espacio más modelos de vehículos lo que llevará desde el punto de vista mercantilista

y se terminará decidiendo la eliminación de aquellas que no sean consideradas estratégicas por los fabricantes

de esto pues pueden ser serán despidos y desempleo

esto es a grandes rasgos lo que ya está ocurriendo cerca de aquí por ejemplo

de barcelona conllevando la posible pérdida de miles de puestos de trabajo y la sensación además de impotencia al no poder los estados en este caso el estado español actuar por no disponer de capacidad

sobre ninguna empresa del sector por lo tanto también la cuestión de la propiedad de los medios de producción sigue ahí sigue siendo un debate de absoluta actualidad pública aunque algunos se empeñen en tildarlo de décimonónico

en su obra conocida popularmente como el capital es una realidad hoy también en el sector de la y es una de las cuestiones que se deben tener en cuenta cuando se debate esto y que se deberían tener en cuenta en esa ponencia la cuestión es

como las instituciones públicas porque de cómo se afronte el futuro del sector

miles de puestos de trabajo en euskadi donde la automoción ya lo ha explicado perfectamente al inicio de su intervención el señor casanova es un sector fuerte es un sector

de nuestra economía la situación en la cav está marcada por la planta de mercedes en vitoria que supone en torno al cinco por ciento del pib de la comunidad autónoma y casi el treinta por ciento del pib de álava poca broma cinco mil trabajadoras y trabajadores más

en plantas de componentes por lo tanto a nosotros

que nos preocupan mucho del devenir de este sector porque lo que pase en el futuro va a tener un importante impacto para bien o para mal

uno de los principales productores de autobuses en este caso una cooperativa que construye además sus vehículos de forma integral desde el año dos mil once

o volvo parece que esta experiencia ha sido positiva hasta el punto de haberse convertido en puntera en el sector con su propio centro

y con una amplia gama de productos híbridos eléctricos y convencionales también

al que ya se ha hecho referencia también en el sector debemos incluir la fabricación de neumáticos también se ha hecho referencia a ella en las anteriores intervenciones en vitoria se encuentra la fábrica de michelin

en basauri y usansolo bridgestone donde trabajan alrededor de otras

y por supuesto la importante industria auxiliar que tenemos en euskadi

unas cuantas y un importante sector solemos discutir sobre cuáles son o no son los sectores estratégicos en nuestro país

hemos escuchado hoy y cuando debatimos también sobre esto en la anterior legislatura está claro que el sector de la automoción es un sector estratégico no hay duda de que al interés general le conviene la acción de las instituciones en relación a este sector

esa ponencia donde puedan participar diferentes agentes donde podamos discutir los grupos también sobre el futuro del sector y sobre cuáles deberían ser los pasos del gobierno vasco sobre el mismo porque sí al gobierno vasco

es el ejecutivo pero al parlamento vasco también le compete discutir y debatir de cuestiones tan importantes y en los plenos el lugar adecuado para esos debates sosegados y para que además intervengan otros agentes al margen de los partidos políticos que deben intervenir

explicando el sector de la automoción tanto españa como euskadi somos una potencia somos uno de los principales productores del mundo pero ninguna de las grandes empresas implantadas en nuestro territorio tiene capital ni español ni vasco ni mucho menos una

pública todo esto nos aboca a un futuro lleno de inseguridades que nos deja a merced de las decisiones que tomen las marcas privadas en países

hacia dónde se dirige el sector y lo que a elkarrekin podemos izquierda unida también nos preocupa mucho dónde se producen los modelos del futuro

en euskadi y un porcentaje fundamental de nuestra economía

y han de afrontarse esas incertidumbres el sector de la automoción en nuestro país es un gigante pero puede ser un gigante con los pies

al no disponer de empresas nacionales ni de participación pública que nos permita tener un cierto control sobre el futuro del sector por eso es doblemente importante que se planifique bien la acción del gobierno y las iniciativas del gobierno

nos hace terriblemente sensibles a los posibles cambios que como hemos visto cambios se van

esta ponencia que apenas pudo arrancar nosotros pensamos que sería enormemente positivo que se ponga en marcha esa ponencia que no tiene porqué durar dos años

y pedimos sobre todo a los grupos que apoyan al gobierno que reconsideren su posición

consejera el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve en esta cámara y por unas circunstancias extrañas al debate en sí mismo debido al cambio de posición

se aprobó una propuesta transada entre euskal herria bildu y elkarrekin podemos apoyada por el grupo parlamentario populares vascos para la creación de una ponencia a fin de proponer

y su fortalecimiento tan importante era el asunto que aprobándose en marzo la iniciativa se pone en marcha a finales de enero de este año es decir

y comenzando la comparecencia el diez de febrero de ese año se disolvió automáticamente cuando el lehendakari toma la decisión de la disolución del parlamento por lo que solo asistimos

entonces sobre la mesa contamos con una nueva legislatura parlamentaria con una respuesta de europa ante la pandemia para la reactivación además económica y

con nuevos elementos que nos pueden dar una visión todavía al menos creemos los socialistas vascos que puedan apoyar más la posición que adoptamos entonces

a reiterar partimos del reconocimiento tanto por parte del gobierno de españa como del gobierno

un sector además que desde el punto de vista tecnológico está bien posicionado como referente y vanguardia en europa en euskadi el sector está representado por el clúster acicae que a lo largo de la pasada crisis la de dos mil ocho

en varias áreas para garantizar la viabilidad de todo tipo de empresas

mejorar la visión estratégica del sector de la automoción fomentar la cooperación entre empresas facilitar la entrada en nuevos mercados y obtener más clientes impulsar la formación y la adopción de nuevos con modelos avanzados de gestión

así como captar proyectos locales estatales y europeos que aporten valor al sector por eso me parece importante poner en valor

el pasado once de noviembre según las cuales el sector vasco

mantiene en la actualidad un nivel de actividad que se acerca al noventa por ciento en algunos casos incluso superior y aunque se prevé una caída de la facturación al cierre de este año

esa directora destaca también su rápida recuperación desde septiembre del sector aunque prevén un dos mil veintiuno incierto y espera que en dos mil veintidós

las empresas vascas de automoción constituyen un sector que el pasado año facturó veinte mil trescientos setenta y cinco millónes de euros sin incluir

álava un cinco coma cinco por ciento más que en el ejercicio anterior y con datos al cierre de dos mil diecinueve este sector daba empleo a ciento veinte mil personas cuarenta mil cuatrocientos ochenta y ocho en el país vasco

tanto en mercados emergentes como en mercados tradicionales se dice además que no es fácil de cuantificar la caída de pedidos que se ha producido en el sector

es cambiante y ahora se está en un momento de crecimiento sustancial debido a múltiples causas en todo caso lo importante en este momento es acabar bien el año y comenzar dos mil veintiuno con igual fuerza decía la señora anitua

a la espera de contar con una foto de conjunto aunque da por hecho que habrá una caída de la facturación

la mayoría de las empresas han sabido capear la situación

esto permitió aprender a reaccionar ante una crisis súbita que supuso una bajada repentina de la facturación del veinticinco por ciento por supuesto esta crisis es diferente

en todos los mercados casi a la vez pero ha servido para relativizar las medidas articuladas desde las instituciones para apoyar a este sector

que se pusieron en marcha en su momento han contribuido a la mejora del sector así también como los aplazamientos de los impuestos o prestamos han tenido una repercusión positiva en este sector y en la actual crisis claro

y en diversificar los mercados clientes productos y procesos del sector

y para ello uno de los elementos más importantes es el hecho

están presentando proyectos para los fondos europeos y aprovechando este instrumento para mejorar su posicionamiento a principios de junio euskadi y otras comunidades autónomas se ponen en contacto con la ministra de industria comercio y turismo

una mesa de la automoción como foro de trabajo para responder a la dinamización de la demanda a través de medidas de rápido alcance y la conjunción de una estrategia

que defina una hoja de ruta por la que vaya a transitar el desarrollo industrial de la automoción y además de solicitar ser parte en la definición de la estrategia con ánimo colaborativo y constructivo las comunidades autónomas avanzaban unas bases que podrían formar parte de la estrategia a desarrollar unos días más tarde el gobierno de españa con el presidente

presentaba el quince de junio el plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción estando presentes en dicho acto agentes sociales agentes empresariales

de este plan este plan es un compromiso del gobierno de españa con el sector de la automoción que se añade a las líneas de prestamos avalados por el estado y a los ciento setenta mil puestos de trabajo que ahora mismo están protegidos bajo la figura del erte

hay que facilitar que el sector continúe adaptándose a las nuevas demandas del mercado nacional también de los mercados de la exportación porque este es un sector eminentemente exportador hay nuevas demandas del mercado nacional

el desafío de la descarbonización con exigencias crecientes de producción de vehículos cada vez más limpios y más sostenibles dos semanas más tarde el veintinueve de junio se constituye la mesa de la automoción impulsada por el gobierno de españa y en la que están presentes los y las representantes de las comunidades autónomas

quien recordó el papel de la comisión europea y su respuesta ante la crisis del coronavirus indicando que la automoción ha sido uno de los primeros sectores en beneficiarse

con la misma capacidad de intervención en el tejido económico y con unas reglas de juego equitativas según el comisario hay que preservar la integridad del mercado interior

que se ve peligrar por los costes suplementarios del distanciamiento social el comisario señaló también que la respuesta a la crisis ha de ser europea y solidaria mencionó los fondos next generation de los que hablábamos ayer y valoró positivamente el plan de impulso

y las iniciativas integradas en el plan nacional integrado de energía y clima consideró que la mesa de trabajo era una iniciativa además de prometedora

valoró la importancia de la mesa de cara al plan de recuperación e impulso de la automoción para definir proyectos tractores que nos permitan escalar iniciativas que refuercen la competitividad de nuestra industria y destacó la importancia de las comunidades autónomas

a toda la cadena de valor del sector de la automoción y de los sectores productivos para desarrollar las inversiones en automoción por tanto hay un claro liderazgo tanto del gobierno de españa como del gobierno vasco para que el sector de la automoción pueda afrontar de forma planificada y coordinada con los intereses de la sociedad los retos de la transición ecológica partimos del hecho de que el sector de la automoción es uno de los principales motores de la economía europea representa el seis por ciento del pib

lo que supone un cinco coma tres por ciento del total de trabajadores por tanto estamos efectivamente ante un sector estratégico de la economía y los gobiernos tanto de españa como de euskadi han tomado parte activa en la elaboración de una estrategia de una planificación estratégica ante los cambios y retos de futuro que tiene planteado el sector de la automoción

a la transición energética en la que estamos comprometidos los países de la unión europea y es por ello

criterios que dimos en la anterior ocasión es por ello que no creemos que la ponencia que se pretende vaya a aportar más certezas prácticas en la definición de los proyectos gracias

tapia andrea legebiltzarkideok egun on guztioi bueno como ya sabrá las personas que han seguido este debate desde el año pasado nosotros nos posicionaremos en contra de la creación

por coherencia con lo que votamos hace un año el marco en principio

político y de debate no ha cambiado y por coherencia también a la acción institucional

en los últimos meses yo hablo de acción institucional porque en los últimos meses o en el mes de junio la consejera tapia le envió a la ministra reyes maroto a la ministra de industria una carta en la que solicitaba una estrategia

y esta carta pivotaba sobre nueve puntos que voy a resumir muy resumidas

la segunda era renovar el parque de vehículos el tercero era desarrollo de red de carga de vehículos eléctricos

la investigación más desarrollo la quinta era más energías renovables la sexta era formación adecuada

la octava era impulsar el vehículo autónomo y conectado y la novena era vigilar las políticas de dumping fiscal

la oposición y particularmente euskal herria bildu y el partido popular ciudadanos

digamos en el timón o cerca del timón en este caso pero creo

ámbitos de acción institucional que tienen que estar protagonizadas

a veces suelo decir un poco irónicamente que es una pena que en china no vean el teleberri porque si en china vieran el teleberri se darían cuenta de que hay una potencia económica que se llama país vasco

que funciona todo de maravilla entonces lo hubieran dado por imposible

pero no ven el teleberri no lo que hace es planificar su economía a futuro

económico muy particular pero también otros países de otro signo político lo hacen por ejemplo korea del sur que también planifica su futuro

planteando aquí que el parlamento sustituya al gobierno entre otras cosas porque sé perfectamente cuál es la correlación de fuerzas que existe en este parlamento igual que el debate de ayer sobre fondos europeos

va a reflejar la misma realidad que refleja la composición del gobierno no estamos hablando de sustituir estamos hablando de dar trasparencia y de dar cauces de participación

a la cámara a los grupos que la componemos y a los agentes de la sociedad civil porque las empresas es probable que estén haciendo

hablamos de mantener el liderazgo si tenían el liderazgo mal no lo están haciendo no lo están haciendo pero las empresas están compartimentalizadas tienen sus objetivos tienen sus sectores tienen sus subsectores

la visión global la tiene que dar un gobierno y la estrategia global la tiene que marcar un gobierno no la tiene que marcar una comisión del parlamento la comisión no pretendía marcar esa estrategia pretendía recoger sus cauces de participación a otros grupos políticos

y entregárselos al gobierno si lo hemos hecho y usted mencionaba otros ejemplos ezkerraldeko

eta logikoa iruditu zait corcuera andrearen yo le voy a pasar su intervención a mi compañero oskar matute para que cuando en madrid hablen de este tema

usted habla del gobierno de españa que ha hecho algo para evitar hablar del gobierno de aquí que ha mandado una carta y cinco millónes más al plan renove durante todo este último año

se le puede pedir mucho más en el presente y en el futuro inmediato y que esos planes estratégicos

sepa le doy la esperanza de que hay una segunda parte sorprendentemente buena que es dos mil cuarenta y nueve

pero en todo caso yo creo que has marcado una hoja de ruta

la cuestión es cómo nos vamos a posicionar porque yo les tengo que decir soy una persona modesta como soy de al lado de bilbao pues voy a decir el más modesto del mundo

esta ponencia no va a diseñar el futuro de la automoción es que millónes de las mentes más brillantes del planeta en estos momentos tanto en gobiernos como en empresas particulares

lo que esta ponencia podría aportar modestamente es una serie de recomendaciones sobre cómo nos vamos a posicionar en ese futuro que ya se está construyendo y voy a poner un ejemplo

que faltaba personal cualificado en determinadas empresas de quién es la responsabilidad de formar personal cualificado cuando hablamos por ejemplo que tenemos un enorme vacío en el software

se adapte habría muchas cosas más que decir evidentemente se ha agotado el tiempo

y recuerde que hubo tres elecciones y varios meses inhábiles por medio por eso esa ponencia se convirtió se alargó antes de ponerse en marcha y luego desgraciadamente se convirtió

ponencias interruptus en la que andaba yo tal y como usted recordó

pero hombre antes de que empezáramos con el tema de las mascarillas que todavía no estaban en uso verdad el gobierno vasco todavía

entendemos que como país la oportunidad de adaptarnos y de liderar

lamentamos que el gobierno rechace las aportaciones de otros parece que bueno que tiene todas las fórmulas

bueno tengo que empezar por decir que el debate me parece muy interesante

que hablemos de este tema aquí en el parlamento en este pleno quiero decir creo que es un tema al que hay que prestarle mucha atención porque efectivamente nos estamos jugando mucho nos estamos jugando prácticamente todo el peso que en nuestra economía actual tiene el sector automoción

el debate por tanto procede el debate tiene sentido pero me parece que lo que no procede es decir crear una ponencia no sé imaginemos que salimos hoy a la puerta del parlamento y nos encontramos con un ciudadano al que le contamos la situación si es que no la conoce y

no sé si esta persona o un empleado de la mercedes se va a sentir satisfecho con la respuesta

seguramente estará todo el sector de la automoción de euskadi conectado por internet para ver este debate y para ver si finalmente sale la ponencia a ver no podemos perder el tiempo con este tema

en la que no tenemos tiempo para estar aquí analizando lo que ya ha pasado

de ver con claridad la situación es bastante peligrosa

seguramente la mayor parte de las fábricas que en euskadi tenemos actualmente trabajando para el sector de la automoción en diez años o han tenido un cambio radical o han desaparecido cuando digo un cambio radical quiero decir que se convierten y si hay una panadería en una pescadería y si hay una zapatería en una panadería es decir un cambio bastante radical

sobre el tema del empleo de forma también radical por ejemplo va a desaparecer empleo no cualificado y va a aparecer si es que lo tenemos

mucha demanda de empleo cualificado y ese tema

con mucha anticipación claro el pnv nos dice que sí que ya han hecho que la consejera ha escrito una carta al ministro para una estrategia compartida

que no puede ser ni siquiera de españa que tiene que ser de europa que seguramente cuanto más agreguemos mejor pero hombre que la solución sea escribir una carta mire no es que queramos estar en el timón

y eso es lo que hoy no vemos muchas gracias eskerrik asko gil jauna elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna zurea da hitza

sí voy a ser yo voy a ser muy breve para básicamente hacer

ciudadanos en la preocupación sobre el futuro a medio plazo de la automoción en euskadi creo que en mi intervención anterior

por eso nos parece importante esa ponencia tenemos tiempo no tenemos tiempo

han comenzado hablando de los consejos de mi madre a los que yo no le hacía mucho caso cuando yo era chaval

pues a veces las cosas son mejor que correr no creo que una ponencia parlamentaria impida tampoco al gobierno hacer las cosas que crea que tenga que hacer en el respecto al sector de la automoción y es verdad efectivamente la gente que está pendiente y las y los trabajadores porque ha hecho usted

a esto en concreto pues no no están pendientes de este debate

tampoco sobre su iniciativa que sí parece que

a presentar un plan estratégico en los próximos meses le seguro que tampoco están ahí esperando

a que el gobierno presente en los próximos meses esa estrategia

que ustedes les piden a nosotros nos parece que el futuro de un sector tan importante que como antes mencionaba es un sector gigante pero puede ser un sector gigante con pies de barro en nuestro país puede ser un gigante con pies de barro en nuestro país

son privadas y por lo tanto la única capacidad de actuación que tenemos son las políticas del gobierno y si efectivamente coincido con el señor casanova

pues estaremos al albur de lo que pueda pasar y además de la transición ecológica de la transición verde y de otras transiciones que

este sector el problema de la sobreproducción que yo he querido poner

nos parece muy importante porque va a tener efectos directos sobre el empleo en euskadi directos muy importantes no sé si en el corto plazo de cinco o diez años pero la mercedes parece que tiene la fabricación garantizada en ese periodo

va a ser de seguramente de esos conflictos que luego nos encontramos con los despidos y que cuando vienen aquí los trabajadores tenemos la bronca

esos conflictos pues ahora es la oportunidad de planificar sobre el sector de la automoción y sí el gobierno

mejor o peor nosotros lo criticaremos lo criticamos pero que el parlamento tenga una ponencia donde los grupos parlamentarios

los agentes del sector donde sindicatos donde patronales donde expertos puedan hablar y efectivamente hacer recomendaciones y poner en el debate público

pues es realmente a nosotros nos parece positivo y nos parece que esa tiene que ser la labor de un parlamento también porque aquí en el pleno en diez minutos no vamos a discutir los grupos

los grupos políticos los que tenemos que hablar y si solo lo hace el gobierno los grupos de la oposición pues estaremos fuera de la ecuación y sí queremos participar también en el devenir de nuestro país entre otras cosas porque la economía y los empleos de él

sí gracias presidenta vamos a ver yo comparto el diagnóstico que ha hecho usted señor casanova en su primera intervención de los quince primeros minutos

su intervención y lo mismo me ocurre con la del señor gil porque ha empezado usted muy bien ha seguido usted muy bien

hasta esa última frase también comparto su diagnóstico

que nosotros tenemos muy claro cuál es el peso del sector de la automoción en la economía y la relación que tiene tanto el gobierno de españa como el gobierno de euskadi con este sector

la rueda de prensa que dio el presidente del gobierno el quince de diciembre presentando ese plan viene en un pdf en la web lo tiene perfectamente el señor matute y estoy convencida de que le va a venir muy muy bien los socialistas

se encuentra ante un escenario de transformación y que hay que tener en cuenta que la energía es un vector fundamental que afecta

pero el sector de la automoción no puede ser considerado como un sector industrial

ni del gobierno vasco le decía yo el quince de junio el plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción

presentando dicho plan en el que en la mesa de trabajo van a participar las comunidades autónomas y el propio gobierno de españa

ustedes y por ustedes por el grupo parlamentario populares vascos se conformó la ponencia en la anterior ocasión

y por eso estuvimos reunidos aquel diez de febrero en esa tarde

era usted pero bueno creo que en fin

por su voto se creó aquella comisión y señor hernández a mí me parece muy bien que usted

casi siempre la razón por no decir siempre pero sabe qué ocurre otro refrán lo que mal empieza mal acaba y aquella ponencia empezó de manera extraña yo no voy a decir mal de manera extraña porque fue

la generó pero lo que no se puede venir es a decir que era muy importante

para el futuro del sector de la automoción y esperar diez meses con elecciones sin elecciones que es igual pero si usted y yo trabajamos muchísimo antes durante y después de las elecciones nos van a frenar unas elecciones para la creación de una ponencia diez meses no señor casanova no no usted sabe a qué jugábamos entonces

y bueno pues lamentablemente empezó de manera extraña y no acabó bien porque acabó con la disolución de esta cámara así que bueno por lo menos para generar un poquito de memoria y buen sabor de boca

pero tiene usted señor casanova todos los jueves y dos viernes al mes para preguntar cuantas cosas quiera y para proponer cuantas cosas quiera de forma

conociéndose actuaciones por parte del gobierno por otra parte

a día de hoy es una de las cincuenta empresas mayores de europa

y por cierto tienen una continuación el triple de cotización que renault

que son fruto de la apuesta de francia por intervenir

el mercado privado el triple también vale el triple una tercera parte

y se está enfrentando a despidos por tanto es un sistema en el cual en ese no no nos vamos a poner de acuerdo eta